egun on denoi eskerrik asko mahaiburu andrea los juegos de azar nos acompañan habitualmente la lotería de navidad la primitiva

acudir al hipódromo apostar al colorado en el partido de pelota la vecina que va al bingo el sábado a la tarde el juego nos rodea y nos ha rodeado históricamente

nos tenemos que preguntar por qué nos preocupa más ahora quizá sea porque en la actualidad jugar es más fácil puede ser más anónimo y el abanico de apuestas es infinito se puede hacer desde casa y es muchas veces un plan

por ello traemos hoy a esta cámara una propuesta que responde a una preocupación latente y extendida en la ciudadanía vasca

venimos denunciando desde hace tiempo en esta cámara que en los últimos años el negocio de las apuestas deportivas y los juegos de azar se ha extendido de forma exponencial por nuestras calles y barrios

y afecta de manera especial a la población menor de edad y a las y los jóvenes de euskadi

el del juego y las apuestas deportivas que nos concierne a todas y que preocupa y mucho no solo a las asociaciones afectadas por la ludopatía

sino a la ciudadanía en general cada vez nos encontramos

de vecinas y vecinos donde en su entorno hay personas con problemas con el juego y existe además un poder de atracción mayor entre los colectivos más vulnerables

que se puede ganar dinero fácil a día de hoy en euskadi hay doscientos cincuenta y seis salones de juego casas de apuestas y bingos once mil trescientos cincuenta y uno máquinas tragaperras

que en su mayoría se encuentran situadas en bares y restaurantes

materia sobre la que existe una alarmante falta de información el mayor cambio que se ha producido en los últimos años dentro del juego

las apuestas a través de cualquier dispositivo las veinticuatro horas del día ese anonimato esa forma de jugar desde casa el vínculo con el deporte que muchas veces sirve de gancho y su accesibilidad a través del móvil hacen que sean muchos los jóvenes que juegan

según los datos del observatorio vasco del juego el volumen medio de la apuesta deportiva online fue de quince euros en dos mil dieciocho mientras que en hostelería y salones

el gasto medio aumenta y es mayor y por lo tanto aumenta el riesgo de que acabe convirtiéndose en una adicción porque todo está montado para que así lo sea el propio séptimo plan de adicciones de euskadi del dos mil diecisiete dos mil veinte ha reconocido

especialmente para la población más joven señalando que el veintiséis por ciento de la población vasca un total de cuatrocientos treinta y seis mil novecientos seis personas ya es jugadora activa

durante el último año en algún tipo de juego de azar las personas jóvenes y los estratos sociales con menos recursos se están viendo afectadas

la oferta de juego se presenta cada vez con más frecuencia en las inmediaciones de centros educativos y universitarios

y a las apuestas y por supuesto a la normalización de una actividad que desemboca en graves problemas de adicción

allí nos encontraremos a varios chavales con sus bolsas de deporte al hombro con la frente cubierta muchas veces de acné

mientras echan un vistazo en la pantalla a equipos con nombres

que muchas veces desconocen y con la que no tienen vínculo ninguno esta escena se repite a diario y con levísimos matices en buena parte de los negocios relacionados con el juego

la mayoría están estratégicamente situados al alcance de los más jóvenes hay más de cien centros educativos y colegios que tienen un salón de juego o casas de apuestas muy cerca de sus inmediaciones hay que señalar también que estas salas de juego muestran una estética atractiva y moderna volcada en el universo

de las consecuencias que conlleva esta dinámica de juego y la cruda realidad es que en estos locales en el fondo solo se puede apostar a perder y en algunos casos a arruinarse la vida según el departamento de salud del gobierno vasco esta realidad emerge al constatar que ya son cuarenta y tres mil personas en euskadi las que presentan un trastorno de juego patológico y que hasta un cinco por ciento de la población joven

el perfil de las personas que acuden a estas asociaciones a solicitar ayuda para problemas con el juego

el trastorno de adicción a los juegos de azar reconocido por la organización mundial de la salud

para su entorno social y familiar y en general para el conjunto de la sociedad y a esto hay que añadirle

la ubicación de estos establecimientos en los municipios de euskadi donde han proliferado es en los barrios más populares y con un poder adquisitivo más bajo allí

es la apuesta segura y con matices este patrón se repite en las zonas de tránsito y en los llamados

y mientras tanto en los barrios con mayor poder adquisitivo no se abre la persiana a ninguno de estos establecimientos y esta cuestión nos tiene que hacer reflexionar no obstante actualmente resulta o ha resultado imposible

ha sido necesario llevar a cabo estudios pormenorizados tal y como reclaman las figuras expertas en adicciones

que debe ser liderada por el observatorio de juego en euskadi es hora de afrontar las consecuencias negativas del juego con medidas concretas y eficaces que aborden este fenómeno de manera transversal en el acuerdo presupuestario

se comprometiese y ya estamos viendo un cambio de actitud respecto a esta problemática por su parte en lo referido a la reducción del número de licencias si bien queda mucho

para acabar con esta lacra que afecta de forma grave a las personas más jóvenes de euskadi y a otros muchos sectores de la población en ese sentido reconocemos que el anuncio

es un buen paso pero no tiene efectos pues que todas las licencias ya estaban concedidas por lo tanto es una medida insuficiente y es el momento es el momento de pasar de las palabras a los hechos

hay una preocupación compartida por parte de todos los grupos y hay que seguir trabajando y para esto elkarrekin podemos para ello para nosotras pasa por alcanzar amplio acuerdo para acabar con este fenómeno que crece de forma exponencial compartiendo en su gran mayoría el diagnóstico recogiendo la preocupación ciudadana y escuchando las reivindicaciones y reclamaciones de muchas plataformas de personas afectadas por la ludopatía

nos toca mirar de frente a la realidad existente en torno al juego

por eso estamos aquí presentando este proyecto de ley porque para nosotras para elkarrekin podemos es necesaria una reforma de la anterior ley reguladora del juego en la comunidad autónoma al país vasco puesto que la norma nos parece que ha quedado obsoleta y en algunas cuestiones

actualizarla aunque mediante el decreto ciento veinte barra dos mil dieciséis del veintisiete de julio del año pasado por el que se aprobaba el reglamento general de juego en la comunidad autónoma de euskadi se abordaron algunas cuestiones necesarias creemos que también

de azar así como las posibles medidas protectoras desde un mayor nivel de profundidad actuando directamente desde el mayor nivel de capacidad normativa es decir

poner coto a esta lacra social la nueva redacción de la ley que proponemos incluye distintos aspectos que en su conjunto pueden suponer un primer paso para afrontar las consecuencias que el juego de azar y las apuestas deportivas tienen en la salud pública de euskadi en primer lugar se propone una limitación a los establecimientos de juego

a sus actuales autorizaciones puede suponer la limitación actual al crecimiento y

que debe ser uno de nuestros objetivos por otro lado se establece un marco horario más limitado que restringe las primeras horas de la mañana y las altas horas nocturnas también se amplía el control de acceso a todos los establecimientos de juego y a las máquinas situadas en los establecimientos hostelería porque a pesar de que tienen el acceso prohibido

y muchos entran después en algún momento del día en ellos además para nuestro grupo parlamentario uno de los ejes fundamentales

es que se recalculen las distancias mínimas entre establecimientos de juego y se añada una nueva limitación respecto a la cercanía y el lugar de acceso de los centros educativos de los centros universitarios y de los centros de tratamiento y rehabilitación de personas jugadoras

donde en un radio de apenas doscientos metros se concentran tres de las cinco casas de apuestas deportivas que funcionan y que operan actualmente en euskadi y esto no

a día de hoy no existe en euskadi una norma específica que impida abrir un salón de juego o un local de apuestas deportivas cerca de un colegio

para luchar contra las consecuencias negativas del juego hay que regular el régimen también de publicidad del juego igual que con anterioridad se ha venido haciendo con el alcohol y el tabaco

que dependen de otras instancias el nuevo ministerio de consumo está ya trabajando en un real decreto que va a limitar la publicidad

en la franja horaria de la madrugada es decir entre la una y las cinco

o no existe el control y hace falta una regulación porque hay un problema social con este tema sobre todo con los colectivos especialmente vulnerables hay que recordar

tienen como portavoces a caras conocidas principalmente deportistas que atraen a las personas más jóvenes

y apuesta a apuesta pueden entrar en una rueda de la que salir resulta mucho más complicado y que muchas veces estos anuncios se emiten o se muestran al lado de anuncios que incitan a pedir y conseguir de manera casi instantánea créditos bancarios

todo son facilidades la trampa funciona perfectamente y el resultado es nefasto pero hay medidas que sí podemos impulsar en euskadi desde elkarrekin podemos abogamos por restringir la publicidad en los medios de comunicación de manera similar así como la cartelería y la publicidad relacionada con el juego

y soportes públicos además adicionalmente en nuestra propuesta queremos establecer un recargo del diez por ciento en el impuesto sobre el juego que iría destinado a la creación de un fondo de prevención y tratamiento de la adicción

además de este proyecto de ley de la necesidad de una profunda reforma de la ley del juego hay que seguir trabajando también en coordinación con otras instituciones

en todos los niveles administrativos que protejan a la ciudadanía

el juego de azar es una actividad económica que no crea riqueza solo consiste en pasar dinero de unas manos a otras está organizado para garantizar el máximo beneficio para el que lo explota y la pérdida casi segura para el que lo juega es un negocio muy rentable

empresas que se dedican a las apuestas deportivas en euskadi por todo esto y ante la evidencia de que la ciudadanía y la gente más joven de euskadi se está convirtiendo en el blanco más fácil para las empresas del juego y en las más perjudicadas

que supone la propagación de la ludopatía desde elkarrekin podemos presentamos hoy esta iniciativa que afronta y aborda de manera actualizada el problema del juego y las apuestas deportivas un problema que desde algunos sectores ya se califica como la heroína del siglo veintiuno

los derechos de las personas más vulnerables a caer en las consecuencias negativas del juego a través de la prevención y la aplicación de medidas de control y sensibilidad de la sociedad

a los intereses económicos de algunas empresas del sector por lucrarse y obtener beneficios sin importar las nefastas consecuencias de un uso irresponsable

se denomina como una pandemia de adicciones al juego se están produciendo diversas protestas

para que este fenómeno se aborde desde las instituciones nos toca recoger el guante ser responsables abordar el problema social que suponen

y hacerlo de una manera profunda y transversal necesitamos un gran acuerdo para una cuestión como esta las empresas de juego

sin embargo no se puede anteponer el beneficio económico al derecho

parlamentarios el grupo popular ha votado a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley

podemos que pretende modificar la ley del juego del noventa y uno son varios los motivos que nos llevan a adoptar esta postura que veo que es unánime en la cámara

de este asunto lo cierto es que en la calle existe un debate existe una preocupación por diversos aspectos fundamentalmente porque es necesario que

a la demanda que nos hacen los ciudadanos de protección de determinados colectivos

al juego no controlado especialmente el de los menores de edad que aunque esté previsto legal y reglamentariamente la realidad es que los menores acceden de una manera no controlada al juego y especialmente al juego en internet un proyecto de ley tan antiguo perdón una ley tan antigua como

no existían y por lo tanto entendemos que es importante que es fundamental traer ese debate que ya existe esa preocupación que existe

fundamentalmente al colectivo de los menores pero también a otros colectivos más desprotegidos que acceden de manera descontrolada

para esta sociedad hay otras cuestiones que tampoco están claramente reguladas dentro de la ley no están perfectamente encorsetadas y que permiten a los gobiernos

reglamentos que regulan determinadas situaciones como son las de la publicidad exigimos desde el grupo popular y así lo haremos si esta legislatura nos da tiempo para presentar las enmiendas oportunas al proyecto que ha presentado elkarrekin podemos para regular todo

exigiendo el cumplimiento estricto de la ley y exigiendo nuevas medidas que contengan esa publicidad que hace que estos colectivos desfavorables

puedan tener esta adicción desmedida al juego por esos juegos simplemente y porque entendemos que es necesario

al proyecto de ley de elkarrekin podemos y tendemos la mano para colaborar en las enmiendas en el trabajo para hacer una ley más moderna más actual y más fácil de aplicar en un futuro muchas gracias

presidenta señorías el país vasco ya tiene una ley de juego

mil novecientos noventa y uno tiene un reglamento tiene observatorio tiene revisiones

se van produciendo lo viene haciendo periódicamente es evidente que existe preocupación y que existe seguimiento y acciones al respecto de toda la problemática que se está generando de la que se ha hablado hoy aquí y de la que se viene hablando anteriores ocasiones es cierto que el aumento de espacios y formas de juego

su afección a las personas más vulnerables que los problemas que genera

que la expansión de la publicidad en general y específicamente en los medios públicos tienen que ser una preocupación constante y efectivamente así lo es

vera que la ley contempla que tiene por un lado los principios estructurales de la regulación y también los elementos de dimensionamiento del sector

en unos márgenes socialmente tolerables haciendo cada tres años una revisión y una planificación las medidas que se proponen en la proposición de ley

obedecen a aspectos de planificación cambiantes y es mejor que estén abiertas a cambios ágiles en su procedimiento que a cambios más rígidos y largos en el tiempo por eso sería razonable detenerse un poquito en el criterio del gobierno sobre la toma en consideración de la proposición de ley que se ha votado y destacar lo siguiente la consideración del gobierno dice así sería más práctico y ventajoso para cumplir con la finalidad que motiva la iniciativa del grupo parlamentario proponente y más coherente con los posicionamientos parlamentarios previos

del observatorio vasco del juego lo cual permitiría una toma de decisión más acertada y acorde a los parámetros jurisprudenciales europeos

en la actualidad o pudieran no tener el impacto que se pretende la limitación del número de establecimientos propuesta

de plazas que contempla es superior al actualmente existente y tampoco afectaría a los salones y locales de apuestas ya que no se aplicaría a los ya existentes y la planificación vigente no deja ya lugar a mayor expansión del número de locales

es en algunos aspectos menos estricta que la contenida en la normativa vigente y en las propuestas relativas a horarios o distancias entre establecimientos o limitaciones

deberían ser estudiadas para evitar efectos colaterales opuestos a los que se pretenden mayor capilaridad en otros establecimientos desplazamiento de juego a zonas periféricas o poblaciones medianas etcétera todas las medidas antes dichas

sin necesidad de esperar al cambio de la ley con el soporte de las conclusiones y propuestas de los estudios del observatorio vasco del juego bien

es evidente como así lo hemos manifestado en la votación que no nos hemos opuesto a la tramitación nos hemos abstenido porque los razonamientos para no considerar esta proposición de ley como algo

son sólidos aunque es cierto que la materia que nos ocupa es importante no queremos cerrar ninguna puerta que se profundice sobre lo que se propone

y procedimientos que se plantean por este mecanismo o por otros que ya están establecidos en legislación actual por eso y siguiendo como he dicho en cierto modo las recomendaciones del gobierno el criterio del gobierno no ha sido claramente

criterio del gobierno ha sido más bien de recomendación y de orientación de otras formas de poder trabajar estos aspectos que se plantean en la proposición de ley

nosotros también hemos optado por facilitar que se pueda tramitar y en el trámite de la misma ya veremos cuál es el camino más correcto para continuar muchas gracias

de juego juegan apuestan a veces ganan pero la mayoría de las veces

casi todos ellos y ellas lo hacen sin ser conscientes del riesgo que ello supone desconocen que la línea que divide la afición a las apuestas del juego a ese juego por diversión que está bien visto socialmente esa línea que divide eso y el juego patológico es demasiado delgada

aisia bezala pero cuidado porque lo que parece un comportamiento normal e inofensivo en muchos casos el juego patológico y el juego deriva en muchos casos en un juego patológico y el juego no es un trastorno de control de impulsos lo hemos dicho muchas veces sino una adicción

en el juego hay tolerancia y en el juego hay síndrome de abstinencia en el caso de las apuestas deportivas estas son demasiado accesibles porque a pesar de que existen locales exclusivos para la instalación de estos terminales el mayor número de apuestas se realizan en locales de hostelería en bares es accesible porque en estos establecimientos no existe ningún control

pues si no existe control lo que hay que hacer es impulsarlo pero parece que el gobierno en este caso ni los grupos que lo sustentan quieren impulsar ningún control lo han demostrado en otras ocasiones y lo han vuelto a demostrar hoy quedándose

tenemos una buena oportunidad para regular todas estas cuestiones por ley porque tenemos una normativa del juego reguladora obsoleta del año noventa y uno del siglo pasado año en el que no existían estas apuestas de terminales deportivos cuántos smartphones había en las manos de los y las jóvenes

una ley no puede regular aspectos que entonces desconocía no solamente esta ley

y hay un mandato de este parlamento que así lo solicita esaten nuen bezala aukera dugu legez arautzeko guzti hau

el gobierno según su criterio así lo interpretamos prefiere dedicarse a realizar estudios y planes que carecen de cualquier respaldo jurídico y que mucho nos tememos se van a quedar en un taco de folios redactados deprisa y corriendo para cumplir expediente y sobre todo porque la oposición ya se lo hemos pedido

o nos tememos que nos vamos a arrepentir de los pasos que en esta onceava legislatura no hayamos dado y no será como decía por falta de impulso de los grupos de la oposición espero que los responsables y las responsables políticas que en lo sucesivo tengan que hacerse cargo de este problema

en algunas de las personas que ostentan cargos de responsabilidad eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea euzko abertzaleak zorrilla jauna zurea da hitza

que como se ha comentado data de mil novecientos noventa y uno del siglo pasado

se modernizó la regulación vigente en un sentido más o menos coincidente con lo planteado en esta proposición de ley es precisamente en dicho reglamento de dos mil dieciséis denominado reglamento general del juego y en la planificación que contiene donde se concretan las limitaciones que se mencionan en la proposición de ley número máximo de empresas número máximo de establecimientos y distancia entre ellos número de máquinas de juego y su ubicación

horarios etcétera ahora bien creemos que el fundamento de tal modificación legal no puede basarse en importar justificaciones que en su caso pudieran ser válidas para otras realidades existentes pero que son bien distintas a la nuestra mientras en algunos lugares donde prevaleció

los locales de apuestas se han multiplicado por seis incluso por más de seis en los últimos cinco años en euskadi la oferta del juego y el número de establecimientos se ha mantenido estable

y a la protección de la salud pública no parece por ello razonable

problemáticas existentes en otras realidades a la nuestra ni querer implantar soluciones importadas sin tener

por tanto entendemos que cualquier modificación de la normativa vigente debe fundarse en estudios técnicos rigurosos sobre el sector y sobre las personas potencialmente vulnerables y a la vez ser jurídicamente segura respecto a las propuestas contenidas en la proposición y sin querer entrar a su análisis que no corresponde en este momento

algunas medidas coyunturales que sería más propiamente objeto de la planificación

de hecho muchas de las medidas que se proponen están ya contempladas en el actual reglamento general del juego o podrían implementarse sin necesidad de modificar la ley con la revisión

del juego que debe realizarse legalmente en dos mil veinte pero con fundamento y motivación en estudios técnicos tal y como exige la jurisprudencia europea y estatal

que en la actualidad ya existe un recargo del doce por ciento es decir mayor que el propuesto pero además

y respetar los posicionamientos parlamentarios previos y en esta materia hay que tener en cuenta la proposición no de ley aprobada por esta misma cámara el día quince de noviembre de dos mil dieciocho y la más reciente de catorce de febrero de dos mil diecinueve aprobada por unanimidad donde también se encargaba estudios y planes al gobierno vasco

el cual recientemente en el mes de diciembre ha finalizado sus estudios sobre el sector socioeconómico del juego en euskadi y la de la ciudadanía además del plan de acción exigido por este parlamento

a la revisión de la planificación y la modificación en su caso del reglamento general del juego dando cumplimiento

el consejo de gobierno el pasado catorce de enero acordó iniciar el procedimiento para la revisión de la planificación del juego que se recoge en nuestro reglamento así como la modificación de los aspectos del citado

y acordó también la suspensión temporal de la concesión de nuevas autorizaciones de juego o modificación de locales de juego durante la revisión de dicha

por lo tanto como decíamos al principio el gobierno vasco está haciendo sus deberes y creemos que sería más interesante esperar a la finalización del trabajo de planificación para los próximos tres años antes de promover una reforma legal y solo nos quedaría instar al grupo proponente a que haga los suyos sus deberes

para terminar sí me gustaría remarcar una serie de ideas que se recogen que se pueden

de esas enmiendas no uno el dinero no es del gobierno

el dinero es de los contribuyentes es de todos vale por el que el gobierno tiene que dar cuenta

ustedes únicamente gestionan el dinero de todos de los contribuyentes

y si no lo quieren hacer si no quieren dar cuenta de esa gestión que es lo que vienen a decir con su enmienda hacen dejadez

no gestionan bien no son buenos gestores mínimamente es otro ejemplo más de su nefasta gestión

que ahora con esas acciones de mejora que dejan entrever en la enmienda intentan esconder no intentan corregir

o por lo menos a mí me genera dudas o lo pongo en duda que quieran corregir viendo que no quieren ni investigar y depurar responsabilidades y dejan entrever en la enmienda

un funcionamiento fraudulento y quizás incluso con implicaciones penales por qué porque no quieren investigar por qué por qué quieren ocultar ah por cierto la señora murga nos habló de un informe que ahora

ni en la enmienda por qué dónde está ese informe los números no cuadran las cuentas no salen

que tiene relación con la denuncia presentada por lab sobre este asunto ante la fiscalía de álava se solicita concretamente

económica sobre las adjudicaciones en las dos cocinas de los hospitales txagorritxu y santiago

y que a dicha auditoría se incorpore el coste económico del material fungible y demás materias primas de los dos hospitales al almacén público de

y por otra parte en un segundo párrafo se solicita que se investiguen y determinen

económica de esta osi en relación al suministro de material fungible y en concreto en lo relativo a la cocina del hospital santiago

que se formuló en el último pleno de control en donde la interpelante preguntaba directamente a la consejera de salud qué medidas se iban a establecer por parte del departamento para esclarecer dichas irregularidades

los argumentos utilizados por la proponente

señalaba que esta cuestión no era una cuestión puntual también se nos explicó como es así

referencia la señora consejera que existe un contrato de proveedor único que engloba alimentos materias y fungibles que para proporcionar las dietas de la osi araba en las cocinas de estos dos hospitales aparte también del hospital psiquiátrico y especialmente este contrato

millónes de euros pero lo que ha traído razón y lo que motivó la interpelación

y el esclarecimiento de estas posibles irregularidades es que la cocina de santiago a pesar de existir este contrato de proveedor único

al margen del contrato en la respuesta de la señora consejera

características de los pacientes de los tres hospitales influye en la gestión del expediente

en los tres hospitales que no se pueden comparar aspectos contables de los distintos centros porque aunque pertenezcan

y se gestionen por el mismo contrato presentan particularidades la referencia

señaló la consejera ella señaló que conlleva muchas peculiaridades por las diferentes dietas y que hasta el año

mediante un expediente de proveedor único mientras que el hospital de santiago realizaba su propia gestión de compras a través de diferentes expedientes y que esta situación

de la osi araba con un expediente de proveedor único para las cocinas de los dos hospitales que como también he dicho engloba la del hospital

es decir los alimentos para elaborar las dietas y el material fungible

del servicio y que se iba a avanzar en la confluencia organizativa de la gestión de las dos cocinas

posibilidad de introducir cambios en los expedientes tramitados y que el objetivo era ir a un responsable único en la gestión de la hostelería

dado por una parte que hay una investigación o puede haber una investigación si se admite la denuncia interpuesta por lab en el ámbito

en dicho ámbito y en primer lugar saber si se va a admitir esa denuncia y que con la admisión de esa denuncia obviamente se iniciará

yo lo que espero y lo que exigiremos es absoluta colaboración por parte del departamento

pero nosotros hemos entendido en este momento que lo más oportuno es que por parte del

se elabore y remita a este parlamento a la mayor brevedad posible un informe concreto detallado

y específicamente se haga referencia y se analice todo lo relativo al servicio de hostelería que analice su funcionamiento la existencia de esas posibles irregularidades que parece que están ahí y las medidas necesarias para subsanar cualquier deficiencia detectada

oportuno esperar a este informe que este informe llegue a la mayor verdad posible nosotros lo vamos a exigir

en un futuro no descartamos que se realice una auditoría externa pero entendemos que es mejor seguir estos pasos que el gobierno elabore ese informe

las conclusiones de dicho informe pues reservarnos también

como ya en este momento ha hecho bildu la solicitud de esa auditoría sin perjuicio como he dicho también

este asunto en el ámbito judicial tengo que decir

los grupos que apoyan al gobierno y de en concreto por parte de la señora larrauri y la señora rojo se me ha ofrecido una transacción

presentada y me voy a referir a algunas de las cuestiones a las que ustedes hacen referencia

que se sigan ejecutando con criterios de transparencia y respetando y aplicando la normativa de contratos del sector público

como no podía ser de otra forma del gobierno vasco y de osakidetza pero también

en este caso cuando estamos hablando de que pueden existir posibles irregularidades no sabemos

parece ser que hay cosas lo que está claro es que hay determinadas cosas y por la información que a nosotros nos llega que no se han hecho bien en la gestión de este expediente por lo tanto que se sigan ejecutando

expedientes de contratación con los criterios de transparencia pues nos parece que es caer en esa autocomplacencia que en demasiadas ocasiones también hemos puesto de manifiesto por parte de nuestro grupo lo de las acciones de mejora nos parece bien para incorporar cambios en los futuros expedientes pero creo que eso también va siempre

en las actuaciones es algo que tiene entiendo que ser algo innato a la actuación en el día a día de este el

habrá que hablar claramente de mecanismos de subsanar esas irregularidades y en su caso también obviamente

creo que me parece insuficiente también como el texto que ustedes me han propuesto como transacción y por ello pues defenderemos nuestra iniciativa

obviamente creemos que es el texto que en este momento pues es el más adecuado

ese informe para detectar esas irregularidades donde están y que se subsanen si así han existido besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak rojo

gracias presidenta y buenos días a todos evitaré a la cámara volver a contextualizar cuál es la situación

la señora ubera y qué es lo que nos trae aquí hoy a este debate y me quiero centrar en puntos concretos porque veo muy difícil llegar a acuerdos porque cuando

encontrar puntos de acuerdo comparto con usted señora

el dinero público obviamente viene de donde viene y corresponde a los ciudadanos

y siempre en beneficio en este caso de la ciudadanía vasca y desde luego ahí tengo que decir que estoy de acuerdo con usted en lo que nos estoy de acuerdo con usted es que parte de un punto de partida de una absoluta desconfianza usted ha llegado a unas conclusiones sin

ni siquiera casi empezado a tratar y desde el máximo respeto a la actividad y a la labor que hacen los sindicatos creo que la labor de un partido político no puede ser únicamente

de que esto llega la fiscalía y todos sabemos cómo llega a la fiscalía y llega la fiscalía sin ni siquiera haber sentado

con el interlocutor necesario por tanto tenemos unos datos que

unos datos que han sido interpretados de una forma concreta pero no se ha utilizado la forma de poder hablar

antes de acudir a la fiscalía decir que además la fiscalía a día de hoy

vaya de que se hayan abierto diligencias por tanto habrá que esperar qué sucede con este asunto esto por un lado por otro lado creo que se utilizan a veces los datos

afirmaciones gruesas sin tener en cuenta lo que esto supone y no es lo mismo la labor que hace un sindicato fuera o lo que hace cualquier colectivo de la sociedad civil fuera

y decir hablar de corrupción de red clientelar de unas prácticas que parece que pueden utilizarse qué estará pasando en las demás osis si se está ocurriendo en la osi araba

me parece señora ubera absolutamente irresponsable en lo que tiene que ver con este tema que ya veremos cómo acaba y responsable por parte de un partido político que tiene una trayectoria como

respuesta que hizo la señora murga en ese pleno de control en el que primero contextualizó de dónde venía la situación y luego explicó cuál era la opinión que tenía el gobierno de qué se podía o qué se iba hacer de lo que yo he leído de una forma creo objetiva

aunque ante lo que está usted planteando ni un intento de justificación es más habla de ese informe al que se refiere la señora garrido que por cierto era el punto que usted planteaba en la enmienda y que usted sabe además que éramos la señora larrauri y yo estábamos dispuestos a pactar con usted esa enmienda porque estábamos de acuerdo con ese informe porque además la señora murga es la primera que lo plantea

por pensar mucho más en réditos electorales y partidistas más allá de proteger la institución y creo que eso también debiéramos cada uno de ponernos en el debe

acusaciones unas veladas y otras no tan veladas por parte de su grupo que creo que aquí todos nos debiéramos hacer responsables de lo que somos capaces de decir

por tanto repito no existe constancia de que la fiscalía haya abierto diligencias entendemos por lo que conocemos que el sindicato por el cual viene esta denuncia desestimó la vía de interlocución

y además creemos que las cosas se podían hacer de otra manera el gobierno vela porque el dinero público se gestione de la mejor forma posible

que presentamos el los dos grupos que apoyamos al gobierno hablamos claramente de tratar esto y todo en criterios de transparencia

las acciones de mejora para la incorporación de cambios por tanto entendemos que todo no se hace bien y que todo tiene un margen de hacer las cosas de otra manera por tanto una enmienda

no lo comparto creo que quizás en otro momento de otra forma se podían haber llegado a acuerdos y luego sí me gustaría plantearle a la señora ubera cuando usted habla de que el dinero es de los contribuyentes que el dinero no es del gobierno dónde ve usted en la textualidad de la enmienda de los grupos

dónde está como que entendemos que esto lo vamos a gestionar nosotros como queramos para los que queramos en esa

además de hablar esconder comportamientos fraudulentos de una serie de cosas que sinceramente

que debieran de sostenerse en algún argumento claro que pueda justificar que estamos aquí hablando de corruptelas

lo que pasa pero en fin por tanto

ni siquiera hemos barajado la posibilidad de llegar a un acuerdo porque se pretende que reconozcamos la posibilidad de unas irregularidades

y no tenemos claro qué es lo que va a suceder esperemos a ese informe del que habla la señora murga para ver sobre qué se sustentan las afirmaciones que dicen del gobierno y de esa forma contrastar con lo que usted dice y luego los datos sobre el que se hacen determinadas afirmaciones interpretémoslos como son de una forma responsable y objetiva

de afirmar creo que estamos en un momento político

pero creo que no debiéramos de utilizar la tribuna únicamente pensando

está por encima de lo que tengamos que decir todos por tanto somos partidos políticos todos responsables y no utilicemos determinadas situaciones bueno pues pensando mucho más réditos electorales réditos partidistas

lo único que están haciendo ustedes es perjudicar a la institución que estaba mejor valorada por los ciudadanos vascos eskerrik asko rojo andrea euzko abertzaleak

jaun andreok egun on bueno hoy debatimos una moción consecuencia de interpelación que se basa en una

que parece que el grupo proponente hace propia y en concreto se refiere a la gestión del contrato de hostelería de la osi araba contrato que incluye los servicios de cocina de ambos hospitales santiago y txagorritxu además de dar servicio al hospital psiquiátrico de araba y el servicio cafetería y en concreto la denuncia se centra

en el en la cocina del hospital de santiago que no sé si o sea la señora ubera

me parece una calificación bastante poco apropiada y respetuosa pero bueno

y está claro totalmente de acuerdo que osakidetza gestiona dinero público pero bueno a estas alturas hacer esas afirmaciones yo creo que tampoco ninguno tenemos ninguna duda y que y que desde luego pues debe primar la buena gestión curiosamente los datos

han sido publicados por la propia osi araba se deben es consecuencia de la política de transparencia de este centro se publican en la intranet mensualmente se publican informes de consumos a los que tienen acceso todos los profesionales del conjunto

que ya se ve que aquí de ocultar de disfrazar nada porque son datos que han sido publicados por la propia

para la denuncia pues el sindicato obtiene unos datos que bueno que sí que son datos detallados pero son se entendemos que se recogen de forma parcial y desde luego sin

es necesario analizar una la documentación en conjunto y

que acompañan a la contratación y desde luego yo no dudo que el sindicato

un trabajo arduo y que le haya llevado varios ejercicios pero desde luego falta es un contraste un contraste mínimo con la entidad y con los responsables que manejan estos datos han acudido directamente

con unos datos a la mínima sospecha no sí de varios ejercicios pero con unos datos parciales directamente a la fiscalía y a los medios de comunicación sin tener ningún interés en que la en que el centro dé las explicaciones oportunas y desde luego se ha insistido ofrecido e insistido en dar esas explicaciones incluso por la señora murga el día de la interpelación en la respuesta a la interpelación del día trece de diciembre y para más abundamiento pues el grupo proponente tiene también solicitadas unas comparecencias

ha esperado a recibir esas explicaciones ni siquiera ha agotado la vía parlamentaria no agota

las vías previas y lógicas necesarias de recibir unas explicaciones y acuden el sindicato directamente a la fiscalía y ustedes directamente aquí con una moción que desde luego no parece que vaya a arreglar o solucionar

la situación si es que hay algo hay algo que solucionar además ustedes

en el escrito de solicitud de comparecencia hablaban de que dé explicaciones de la denuncia de lab hombre de la denuncia de alguien deberá dar

entiendo que estaba que era se refería a una mala a una

auditoría solo de este contrato y además exigen que se depuren responsabilidades como es obvio no podemos estar de acuerdo con estas solicitudes no podemos no estamos de acuerdo en que se solicite una auditoría así de saque hay medios o sistemas procedimientos previos que se deben explorar y no podemos por cada sospecha o por cada dato

porque unos datos en un momento determinado no cuadren y para nada hay aquí falta de actitud o de oficio de

se están tomando medidas no en este contrato solo sino en la mejora continua de las contrataciones

y en cuanto a las responsabilidades que ustedes hablan hombre pues de momento sigue en vigor el principio de presunción de inocencia invertir la carga de la prueba pues no nos parece muy responsable y se están hablando de unas acusaciones gravísimas

ha hecho unas acusaciones gravísimas que por una mínima responsabilidad y prudencia se deberían tener una base por lo menos más sólida y en cuanto al grupo popular bueno pues también habla de irregularidades que en lo que no estamos de acuerdo que se hable de saque y de irregularidades

la señora murga en su interpelación del día trece de diciembre ya

la dirección económica financiera que está

para elaborar ese informe con lo cual en cuanto al informe ningún problema y la consejera en aquel momento también

las materias o los productos fungibles y no quería ningún otro tipo

es necesaria y oportuna compartimos de hecho me remito porque no voy a ser tan extensa como en su día fue la señora murga pero desde luego sí influye el proceso de integración de las osi los contratos la unificación de contratos influye en la complejidad

de la interpretación para poder gestionar interpretar esos contratos con una dificultad altísima y desde luego

las diferentes culturas de los centros todo influye y

de ambos centros y además también hay que destacar la exitosa

de la osi araba a pesar de que ha sido un camino difícil y en algunos aspectos se podría decir que hasta traumático pero ha sido y sigue siendo un reto que desde luego la exitoso que pero desde luego el centro es consciente que todavía quedan en muchos aspectos a mejorar y así nosotros también

pues seguir avanzando que se sigan que se adopten medidas para que se siga avanzando en la confluencia organizativa de los hospitales de santiago y txagorritxu y así seguir mejorando

pública por lo tanto no nos parece nada responsable ni prudente ni justo

se vaya a la fiscalía y a los medios de comunicación directamente sin haber existido

mínimo y usted lo sabe señora ubera no ha interesado y

es tirar por la borda unos esfuerzos el esfuerzo el gran esfuerzo que ha supuesto la integración y la buena gestión y en genérico pues la en general la buena imagen o la buena imagen y en lo que se refiere a la fiscalía bueno no tenemos constancia a día de hoy de que se haya admitido la denuncia pero como no puede ser de otra forma y como también anunció la señora murga

no duden que se colaborará que se prestará toda la colaboración

compañera murga compañeros y compañeras parlamentarias egun on guztioi voy a intentar no repetirme y solamente y de forma muy breve voy a plantear algunas líneas de reflexión sobre

organizaciones sindicales del hospital de santiago y del hospital txagorritxu al parecer presentaron ante la fiscalía creo que de bilbao no de álava documentos

la compañera rebeka ubera haciéndose eco de dichas denuncias presentó una interpelación sobre el asunto y esta moción consecuencia de ella pidiendo una auditoría de la gestión económica de la osi araba

así como la de responsabilidades de la dirección económico financiera de dicha osi

a nuestro grupo parlamentario la compañera ubera no ha informado de los hechos no nos consta ningún documento

las hemos escuchado se han repetido aquí tres veces ya no las conocemos los agentes sindicales que han presentado en fiscalía la denuncia tampoco me recuerda cuando vinieron a vernos los anestesistas roberto y marta a cristina y a mí y nos dijeron está habiendo filtraciones de exámenes en osakidetza y yo le dije no me digas hace mucho que lo sabemos

elkarrekin podemos no hizo nada hasta que los anestesistas

los informes del notario es por ello por lo que no hemos presentado una enmienda a la moción aunque damos las gracias especialmente

la información y la insistencia en explicarnos su posición sin embargo vamos a apoyar la propuesta de esta moción y

estamos en otro ciclo político debemos estar la desastrosa gestión de los casos de las ope fraudulentas aún judicializados

en base a prevaricaciones debe aportar sus enseñanzas no nos pueden dejar indiferentes precisamente para no volver a repetirlos corrupción cero

agilidad en detectar los problemas si yo fuese director gerente de la osi araba ante los mismos indicios de supuestas irregularidades

una auditoria interna con la discreción necesaria siempre claro

que se iba a elaborar un informe y de hecho parece que hace un tiempo ya una comisión está investigando el asunto no tenemos ninguna información

ni sobre la investigación de dicha comisión para conocer la realidad de los hechos y sus responsables y tomar las decisiones que correspondan es lo normal

responsable de cualquier unidad de gestión escuchar los agentes sociales y actuar con responsabilidad y con la agilidad es necesario llegar siempre

debates parlamentarios sobre asuntos de supuestas corruptelas es conocido por todas y por todos que las llamadas

si no se evalúan sistemáticamente de acuerdo con los términos que constan en los pliegos de la concesión

son susceptibles en múltiples ocasiones de corruptelas tanto en la gestión de personal y su prevaricación como en la gestión de los recursos asignados eso ya lo conocemos

ante los indicios o sospechas de irregularidades contables quién puede estar en contra en estos momentos de una auditoría interna

interna o externa el psoe ya ha dicho la posición clara natalia rojo el pp

y nosotros todos estamos de acuerdo que ante sospechas o indicios

se analice la situación el asunto está ya judicializado qué recorrido va a tener no sabemos por qué apoyamos la moción que presenta la compañera rebeka

todos los grupos lo han dicho lo que pasa es que unos grupos lo han planteado de forma interna y otros grupos lo han planteado de forma externa

sí ya lo dijo la consejera que se va a hacer un informe de investigación interna sobre el tema no tenemos ninguna información ningún dato

irregularidades de las sospechas permanentes de corruptelas de no evaluar como corresponde la denominada colaboración

ya no podemos ni debemos mirar para otro lado como bien sabe el consejero erkoreka

farmacia seguro escolar complemento de pensiones nuestra administración pública vasca

sino para los retos de detectar de forma ágil democrática

los indicios las sospechas los problemas de irregularidad de la administración pública vasca que bastante complejidad tiene

tener instrumentos de evaluación sistemática y tomar decisiones rápidas de nuestra sensibilidad democrática de nuestra agilidad en tomar decisiones oportunas en cada momento oportuno de nuestra capacidad de transparencia y democracia

adecuada del gobierno y también de la oposición

y para el resto del estado español por eso apoyamos la moción porque es una

y el resto grupos parlamentarios pues hombre apoyamos que hagan lo mismo que de una manera o de otra lo han planteado si bien no apoyan los que han intervenido la auditoría externa que ha planteado la moción

información sobre los hechos auditoría interna o que el informe que la consejera nos planteó

señora rojo usted se ha convertido en la defensora de las causas perdidas

desconfianza no nosotros lo que pedimos es auditoría investigar

hubo reunión en la que el gerente no apareció y si quiere le digo quiénes estuvieron en esa reunión qué responsables estuvieron en esa reunión hoy he visto la misma actitud y modo de actuar

recuerdan lo que está pasando en la ope recuerdan ustedes siguen igual eta hemen

destituzio estali bat una destitución encubierta

para no hacer público la destitución para no asumir responsabilidades qué pasa cómo funciona este gobierno cómo va el tema de la asunción de responsabilidades públicas

ere por eso le decía señora larrauri

usted en su enmienda de transacción ustedes no hacen referencia a ningún informe hablan de establecer mejoras hablan de seguir actuando con criterios de transparencia si todo eso está muy bien todo eso se presupone en una actuación del gobierno vasco y cuando se gestiona dinero público pero no estamos hablando de eso estamos hablando

y sobre todo que se ha podido actuar y se ha podido hacer una provisión de material al margen de un contrato que engloba la previsión de dicho material y por lo tanto creo

una denuncia por parte de un sindicato sea el que sea ante la fiscalía la fiscalía dirá lo que tenga que decir veremos si esa denuncia se admite a trámite o no si se inicia un procedimiento en el ámbito judicial el que corresponda

parece ser que no hay inconveniente o yo entiendo que no ha habido inconveniente por parte

la señora consejera de verificar la situación de ese expediente y de ese contrato yo no sé si el análisis de ese contrato en concreto ha sido a raíz de la presentación de la denuncia de la fiscalía por lo tanto si ese anuncio se hace después de la presentación de la denuncia ante la fiscalía este grupo comprenderá que también entienda que el propio gobierno entiende que puede haber cosas que no se hayan hecho bien por lo tanto yo creo que lo que corresponde en este momento es que el gobierno vasco elabore y nos remita a esta cámara ese informe a la mayor brevedad posible que es lo que solicita este grupo pero no un informe cualquiera

en el que se aclare si ha habido irregularidades o no

se pongan los medios para subsanarlas las mejoras correspondientes en el conjunto de la contratación y del expediente

responsabilidades que se asuman y la vía judicial obviamente

que dado que hay una comparecencia solicitada ya por un grupo en esta cámara que es el mismo que ha traído la interpelación y la moción pues hombre sería conveniente digo

se explique por parte de la consejera este informe nosotros vamos a ser exigentes con la petición de este informe y desde luego si no nos satisface este informe pues sí que obviamente estudiaremos otras vías como son las que se proponen aquí por el grupo que ha planteado

pero pasos firmes y no vamos a despistarnos del camino y el camino es ese informe que nos aclare si ha habido irregularidades o no y si ha habido irregularidades dónde están

dónde han estado las negligencias y que también se subsanen y si ha habido irregularidades obviamente que no vuelvan a ocurrir eskerrik asko garrido

gracias presidenta mire señora ubera defensora de causas perdidas por estrategia partidista ni una es que yo creo que usted no entiende el papel de los partidos políticos y no sabe diferenciar cuando uno está gestionando y cuando otro está en la oposición usted se ha dedicado toda la legislatura a incendiar la comisión de salud

pues entonces ahora ha cogido esto lo coge con pinzas lo coge con pinzas señora ubera porque creo que está clara la explicación que dio la señora murga otra cosa es que usted no lo quiera entender

partidista sobre qué puede sacar en beneficio con este tema en este caso de la comisión de salud

aquí estamos para velar por que las cosas se hagan bien bien señora ubera bien y usted nos cuenta a veces cosas a medias efectivamente hubo una reunión el dieciocho de noviembre a petición del sindicato lab y se reúnen con ellos

cuando llegan allí se plantea el tema se les dice para reunirse el día diecinueve al día siguiente de una forma más detallada y más tranquila cuando saben efectivamente de qué se quería hablar qué dijo lab que no se les vuelve a convocar

qué dijo lab en la segunda ocasión que no entonces contemos las cosas como son

hubo una sin saber de qué se iba a hablar y hubo dos propuestas que el sindicato se negó señora ubera

porque la labor del partido socialista no es criticar la gestión de ningún sindicato

estamos en contra señora ubera no se puede hacer política únicamente haciéndonos eco de lo que algunos sindicatos hacen cuando interesa hacer y sobre todo atándose a lo que está pasando en osakidetza para hablar de cosas que no tienen fundamento eso una

usted formó parte del acuerdo más importante a raíz del problema de las opes usted formó parte

todos los puntos menos uno pero no le sirvió el pacto y no ha respetado lo que allí se acordó y ha seguido incendiando y incendiando el tema de las opes señora ubera por tanto

responsabilidades que no son seguimos qué está haciendo osakidetza está haciendo lo que debe hacer

gestionando lo que le corresponde el gobierno está intentando resolver los problemas donde hay haciéndolo de la mejor forma posible

no me ha argumentado nada para sostener corruptelas redes clientelares es que la consejera se esconde que no sé qué nada frases gratuitas grandes titulares de periódico que lo único que hacen es

es que no es verdad y me parece que todo no vale el informe señora garrido

que el informe fue la señora murga la que lo planteó usted ha cogido la interpelación y ha planteado aquello en lo que ve la posible solución

y luego usted ha vuelto a hacer lo que hace muchas veces una de cal y una de arena querer criticar al gobierno

y querer criticar al gobierno mucho en la segunda dejándole

con su intervención vote a bildu por qué no ha firmado una enmienda transaccional

está más cerca de los argumentos de la oposición lo que pasa que cuando uno quiere quedarse en el centro hay que prepararse muy bien el argumento y no tiene nada que ver lo que usted ha dicho al principio

y nada que ver por supuesto con el voto que va a ejercer usted cuando llegue el momento de la votación implantar mejoras decían

que no lleva implícito corrupción que quede claro que no lleva implícito que las cosas se han hecho mal que se ha escondido que esto es opaco

que se puede mejorar solo faltaba que llegara aquí la consejera y dijera que osakidetza es la panacea en la que tiene que mirarse el mundo mundial que no

que hay actitudes corruptas perdóneme pero es que yo no lo veo no lo veo y si no justifíquelo baje aquí y justifíquelo y luego

debíamos ser un poco más responsables con todo esto que sucede y cuando alguien considera que hay una actitud que puede ser un delito efectivamente para eso está la fiscalía pero hay que saber separar el papel de la fiscalía

y el papel de los partidos políticos porque lo que nosotros décimos aquí lo que aparece en las actas y lo que firmamos

que no tienen esas reuniones que parece que hay pero que no hay y sobre todo digamos la verdad y contemos las cosas como son una reunión sin saber de qué se iba a hablar dos propuestas y dos negativas por lo tanto a ver quién se ha negado aquí a la interlocución

y fiscalía en vez de informarse e intentar resolver

pues aquí no ha habido ningún interés en recabar información en contrastar el asunto y que se ha acudido directamente a la fiscalía y a los medios de comunicación y lab y

ni el grupo proponente han tenido ningún interés ni han perdido ni un solo minuto en querer recibir en querer aclarar la situación con los que tienen con los que pueden dar explicaciones sobre ello y han acudido directamente a la fiscalía y a los medios de comunicación y es curioso que el grupo proponente en este caso eh bildu evite no el diálogo

corriendo a judicializar el asunto y yo creo que

acusaciones no tienen rigor es verdad que existen unos datos que parece que no cuadran pero desde luego no el rigor suficiente para las acusaciones que se está que se están haciendo y tengo mis dudas que muchos de los que están hablando aquí

unos hechos que tan graves se hayan leído esos informes de consumo se hayan leído incluso la documentación que en este momento

y en cuanto a la auditoría o la auditoria o nada o la auditoría o todos serán responsables bueno yo creo que ahí desde luego hay otras vías

hay que explorar primero otras vías desde luego

se están poniendo medios para que las contrataciones en general

la señora murga las irregularidades pues aquí se está hablando ya de irregularidades responsabilidades

aquí no es ya la presunción de inocencia no está vigente aquí es culpable se demuestre lo contrario no no parece lógico ni sensato

y al final no olvidemos que estamos desprestigiando

actuaciones y en cuanto y luego usted señora ubera dice es que la se dejó de hacer en el momento de la denuncia se dejó de hacer se cambia de actitud o

actuar con cautela no está mal y modificar modificar

de la macro corrupción hombre yo creo que ahí hay un salto

en cualquier caso la situación se está analizando y se están poniendo medios para seguir mejorando y en cuanto al grupo popular pues efectivamente el informe que

en la respuesta a la interpelación es que es literal el informe detallado que está realizando

le pone unos apellidos de posibles irregularidades

en aceptar ese tipo de calificaciones pero es que el informe no se lo no es

suya es lo dijo lo ofreció lo informó sobre ello la señora murga y en cuanto a la postura del señor uria pues realmente yo se lo digo con respeto y le tengo aprecio en lo personal pero es que

después igual pasaba por la del partido popular y acaba apoyando la de bildu yo la verdad que su votación

entiendo que por las ramas y acaba votando la de bildu que para mí desde luego no coincide con la exposición que estaba haciendo usted yo a usted le he visto que ha empezado

auditoría y aquí en cualquier sospecha auditoría hombre matar moscas a cañonazos y las auditorías por cierto son externas

conllevan gasto público que ustedes hablan de las externalizaciones pero por si acaso

una auditoría externa no nos valen los medios propios para esto

pues un poquito de prudencia no estaría mal y yo lamentablemente parece que al final aquí lo que prima es el desprestigio

esta reflexión que ha hecho la compañera larrauri

si la dirección de la osi araba hubiese realizado una auditoría interna una comisión de investigación un informe en su momento nosotros no hubiesemos apoyado la moción

buenos días egun on señora presidenta señorías consejeras lehendakari bien en el trámite de aprobación del proyecto de ley de patrimonio cultural de la comunidad autónoma vasca se dio una circunstancia fue muy curiosa por poco habitual no el proyecto de ley

una propuesta del gobierno regulaba el consejo de patrimonio cultural de euskadi y su composición sus miembros y sin embargo en el debate

la regulación legal el proyecto de ley proponía formando parte del texto legal se rebajó la regulación legal del citado consejo pues a regulación reglamentaria o sea que el gobierno pues a su discreción pues aprobase

del consejo de patrimonio cultural de euskadi de sus

importantes dentro del desarrollo de una ley que también se considera importante que era la ley de patrimonio cultural de euskadi bien

propondrá el consejo y sus miembros no nos pareció una buena decisión ya que hubiesemos preferido

de la ponencia pues nutrir en el propio texto legal al consejo de las personas idóneas para formar parte del mismo no en teoría pues representantes de instituciones o de ámbitos

y yo mi grupo con la interpelación al señor zupiria y con esta moción yo quiero tratar de influir en la decisión definitiva al gobierno vasco en la aprobación del futuro

y en la decisión de integrar a personas idóneas en la defensa del patrimonio y a personas expertas de todos los ámbitos posibles dentro de lo que tiene sustancia

y en la defensa del patrimonio y en el conocimiento del patrimonio cultural

pues daba cabida y lo hará el decreto suponemos siguiendo esa línea argumental del proyecto de ley

el gobierno está muy bien representado de acuerdo también a las diputaciones forales

que trabajan en la materia cultural en muchas de sus expresiones no y ahí están algunas de las que nosotros pues identificamos en aquel momento y seguimos identificando ahora por eso

trata de que sea aprobada como de influir de alguna manera en la decisión que el gobierno pues tome en su momento en relación con esa composición del consejo

y hay otras universidades en este país expertas

vinculada a través de las letras a través de la historia a través de las ciencias sociales

al patrimonio cultural no o sea que en ese sentido hay más universidades además de la upv que se pueden que pueden integrar para bien ese órgano que trata de ser

en lo consultivo en relación con los informes que puedan evacuar en una materia pues tan importante como el patrimonio cultural en todas sus expresiones y en todos sus ámbitos y en ese sentido

hay personas idóneas y a nosotros nos gustaría que en el decreto definitivo nos hubiese gustado que hubiesen estado en la ley definitiva que no fue así y en lo que respecta pues también a las diócesis de la iglesia católica

pues propietarias todas ellas de un ingente patrimonio cultural artístico religioso

en el proyecto ley en lo que era la composición del consejo vasco de patrimonio cultural y sin embargo las propias diócesis tienen auténticos expertos en que velan por ese patrimonio que velan por ese patrimonio que lo conocen que lo cuidan que saben

también podían integrar un representante de todas esas diócesis que nosotros conocemos hemos estado con ellos en lo que es

regulación de la ley de la fase de ponencia de las enmiendas sabemos que hay gente que conoce muy bien el patrimonio cultural no y

también tienen que estar de alguna manera integradas en ese consejo asesor es decir y por eso le damos importancia al consejo de patrimonio cultural

también vinculadas a las diócesis bien pueden asesorar y formar parte del trabajo del órgano referido

en la futura actuación del gobierno a la hora de redactar ese decreto

del patrimonio cultural por eso decíamos en nuestra moción que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que en la definitiva composición del consejo de patrimonio cultural

con facultades y grados de letras o ciencias humanas y sociales donde forman parte todos esos catedráticos profesores en un ámbito muy ligado a la defensa y al conocimiento y la investigación del patrimonio cultural

y de las diócesis vascas propietarias y conservadores de un rico patrimonio cultural bien esta moción pues era clara era puntual ha tenido algunas enmiendas y no están mal las enmiendas de la señora garcía o del señor estarrona pues también bueno lógicamente

como criterios de determinado tiempo composición equilibrada nos parece pero no entran a lo puntual o no entran a lo concreto desde luego que nosotros pretendíamos pues bueno pues ahí están pues instar al gobierno a que lo presente

expertas pero bueno por eso nosotros hemos concretado claro que sí que lo estén todas las expertas pero algunas que no formaban parte

que no está mal pero en cualquier caso era difícil hacer una transacción lógicamente porque no porque lo nuestro

una enmienda de transacción que recoge lo que le decía fundamentalmente la señora garcía y el gobierno pues bueno

es influir nos da igual que se apruebe o que no se apruebe nuestra moción queremos influir porque lo tiene que hacer el gobierno es decir y en ese sentido

que recoja el señor zupiria y presente en esta sesión esta propuesta más que

que mantuvimos no nos parecen mal las enmiendas pero en cualquier caso nosotros queremos que en ese ámbito

con gestión en materia cultural y en materia

sociales y humanas con catedráticos con profesores expertos en la materia de patrimonio cultural y las diócesis vascas con muchos expertos además un patrimonio cultural y además diócesis propietarias de la mayoría

estén integradas en ese órgano tan importante como va a ser el consejo de patrimonio cultural de euskadi muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

iniciativa muy concreta que en torno a la composición del consejo de patrimonio cultural

que además viene de una interpelación y de una petición

y nosotras enmendamos entendemos además que esto parte es una iniciativa que llega ocho meses después de la aprobación de una ley que en su mayor parte es una ley trabajada con consenso y además

del trabajo que se realizó durante la ponencia para lograr una ley que entendíamos que albergaba diversas sensibilidades y que realmente era necesaria para la conservación

en euskadi es verdad que después de ocho meses ha habido tiempo suficiente para el desarrollo del reglamento también es verdad que en esa ley que aprobamos en mayo ya se hablaba de que la composición

de ese órgano al margen del desarrollo reglamentario tenía que ser

integrado por personal cualificado de las diferentes instituciones y que además

que tuvieran que ser consultados o que fueran estudiados las personas o las profesionales expertas en determinadas materias fueran llamadas

una composición abierta flexible que además integraba a todos los sectores que no dejaba a nadie fuera y además una aportación que nosotras hicimos y que por eso la volvemos a llevar hoy en la enmienda

hubiera paridad tanto en la propia composición

que se crearán para los diferentes casos que fueran surgiendo así que tal y como nosotras lo trabajamos y lo acordamos en la ley

el señor barrio realizamos la enmienda en los mismos términos es verdad que en el resto de enmiendas se hablaba de plazos y es verdad que para elkarrekin podemos ocho meses

estamos de acuerdo creemos que el gobierno ha tenido tiempo suficiente como para poder desarrollar el reglamento y establecer unos criterios

en la ley de patrimonio cultural por lo tanto no no hay mucho más que decir nosotras hemos transado

una iniciativa junto con los grupos que apoyan al gobierno porque entendemos si bien tenemos que ser críticas

no sabemos si la legislatura va a acabar esta semana va a acabar dentro de unos meses en cualquier caso independientemente de los tiempos tenemos que tiene que quedar muy claro que sí ha habido tiempos suficiente para el desarrollo de ese reglamento que de alguna forma tiene que suponer esto

tareas que tenían que haber realizado y además dado el espíritu de una ley que como bien sabe partía de un consenso importante y partía de un acuerdo importante

para desarrollar aquellas cuestiones que se abordaron en el articulado de la ley al margen de eso entendemos y damos un voto de confianza a que

se produzca con la mayor premura posible reivindicamos que además haya una

la composición de los miembros entre los hombres y las mujeres no solo en el propio órgano

y por ello hemos firmado la enmienda de transacción eskerrik asko eskerrik asko

nosotras desde eh bildu sí que planteábamos de alguna manera que bueno se hiciese un contraste previo

decreto que articulara y definiera el funcionamiento del consejo de patrimonio vasco por una sencilla cuestión

existiendo un ámbito un órgano con tanta gente profesional con catedráticos

forma parte también de alguna manera del funcionamiento del gobierno vasco de una misma administración qué mejor que aprovechar

recibir contrastes y poder enriquecer la propuesta que se puede hacer desde el mismo

o sea porque en cuanto a las funciones del consejo vasco de la cultura sí que se establecen que se pueden proponer medidas que favorezcan la actuación coordinada en materia de cultura y yo creo que esta es una de las medidas recogidas en la ley que se vaya a desarrollar implementar posteriormente que favorecen la actuación coordinada

y por otro lado en su apartado c del artículo octavo también se recogen estudiar y analizar cuantas cuestiones se refieren a la protección creación formación producción y difusión cultural por lo tanto creo que entra de manera muy lógica en las funciones del consejo vasco de la cultura que por cierto tampoco está funcionando como debiera

también otro ápice o punto de crítica y por eso nosotras planteábamos esa cuestión en nuestra enmienda que parece ser que no va a ser aprobada porque están los grupos del gobierno junto con elkarrekin podemos que han hecho una transaccional que lo que decía el segundo de los puntos no atiende a nada porque ya está recogido en la ley por lo tanto no aporta nada a este debate

al gobierno ni obliga al gobierno absolutamente nada que no tendría que hacerlo y el primero de todos

es decir estaríamos hablando ya de año y medio seguramente para desarrollar un decreto un reglamento de composición de un consejo y lo he dicho antes creo que ya he comentado que nos parece un poco incomprensible la inacción o la tardanza de este decreto de este reglamento

de atención al gobierno también para que se ponga las pilas y nos parece que año y medio y retrasar más

gracias presidenta buenos días consejeros consejeras

guztioi bien el representante del partido popular nos trae hoy esta moción consecuencia de interpelación derivada de aquella que se sustanció en pleno de control del pasado trece

en aquella interpelación el representante del partido popular el señor barrio

insistía aparte de recordarnos el devenir del proceso de elaboración

insistía como digo en la idea de que el hecho de que la composición organización funcionamiento y funciones del consejo de patrimonio cultural de la comunidad autónoma vasca se regulara vía decreto iba a suponer lo que él calificaba

una rebaja legislativa curiosa si no está mal

y hoy en la moción que ahora tratamos únicamente se insta al gobierno vasco fundamentalmente bueno fundamentalmente no a incluir

con una presencia nominal como decía el señor estarrona a miembros de la universidad de deusto y de las diócesis vascas en este caso en esta moción

en tela de juicio esa posible depreciación desde el punto de vista del carácter normativo ni tampoco la

nada un artículo señor barrio que por cierto establece taxativamente que dicho consejo estará integrado por personal

y por personal técnico especialista o representante de los sectores profesionales que actúan en el ámbito del patrimonio cultural sin adscripciones y sin exclusiones no habla pese a que es de manera nominal

una gestión integral del patrimonio cultural una gestión que contemple la identificación la documentación la investigación la conservación y la protección pero que haga también explícito el compromiso con su transmisión fomento y puesta en valor

a través de este modelo más eficiente de protección y fomento de nuestro patrimonio garantizando como decía la transmisión conocimiento y disfrute a las generaciones presentes y futuras no es necesario recordarlo porque ya lo han hecho ustedes también pero sí es oportuno me parece

efectivamente contó con un amplísimo respaldo en este parlamento y hay que recordar también que fue votada sin ningún voto en contra y en definitiva lo que planteaba el representante del grupo popular el grupo popular lo único que está planteando es no es otra cosa

que intentar mediante esta iniciativa conseguir lo que no logró

enmiendas en el proceso de elaboración de la ley no lo consiguió entonces y tampoco lo va a hacer hoy señor barrio pero lo que sí puede desde luego es todavía y está tiempo de sumarse a una enmienda de transacción que efectivamente hemos firmado el grupo socialistas vascos el grupo nacionalistas vascos y el grupo elkarrekin podemos

apruebe ese decreto que regulará el consejo de la cav de patrimonio cultural añade un segundo párrafo que a mí no me parece en absoluto

en fin que no sea necesario recordar siempre y es que el decreto deberá sustanciarse en los términos descritos en el artículo cuatro de dicha ley e incentivará

en dicho consejo en este caso cualquier comunicación en este sentido o cualquier manifestación en este sentido me parece que es absolutamente necesaria porque además tiene que ser así y no puede ser de otra manera en una sociedad como la nuestra que se pretende

de que se proceda a elaboración y publicación del decreto para dar cumplimiento a lo preceptuado en la ley y yo creo que el debate
no da más de sí así que de manera y sin otro particular muchísimas gracias eskerrik asko gallástegui

ley que nació con tanto consenso surgiera toda esta estela de debates además en pleno que está trayendo usted dice usted que para influenciar quién influenció ya lo hizo en la ponencia

la que modificó el proyecto de ley como ha explicado usted y bueno lo cierto es que a la mayoría de la ponencia porque el objetivo que se perseguía

y que a la hora de tratar los temas en el consejo si se hablaba de retablos

y si se habla de versolarismo pues exista haya personas en esa mesa que supieran mucho de versolarismo este es el objetivo último

del decreto que se hará público que se aprobará

al gobierno hacia un trámite burocrático que le supone alargar plazos o que le supone más trabajo administrativo el gobierno está interesado en que ese consejo funcione y por tanto bueno ya veremos a ver cuando publiquen el decreto pero en principio

estos preceptos de hacer un consejo flexible y que reúna alrededor de esa mesa a gente que realmente sepa de los temas que se tratan en el orden del día se

un consejo que sea una especie de contrapoder institucional a la institución tampoco tiene que ser un consejo que sea una especie de junta de accionistas donde cada propietario de los bienes defienda sus intereses particulares de forma legítima sino que es algo que tiene que ir mucho más allá legearen garapenari dagokienez

las cosas en las que uno cree que está aportando o que está

dar una sensación de insistencia pero hay que pelearlas porque pensamos que lo que estamos haciendo va a aportar a la defensa del patrimonio cultural vasco o sea que por eso lo hacemos el señor estarrona habla de que

preponderante de la iglesia en el consejo de patrimonio cultural no no yo quiero el lugar que le corresponde por capacidad por gestión de ese patrimonio por experiencia por tener a personas expertas por eso quiero que esté

no quiero nada más de lo que le pueda corresponder con normalidad

de lo que gestiona y de todas maneras ha mezclado

las inmatriculaciones es decir en el país vasco no existe ninguna inmatriculación mal hecha

ni impugnada eso es muy importante señor estarrona muy importante o sea que téngalo en cuenta porque claro para criticar a un colectivo en base a cosas que pasan en otros sitios o en base a figuraciones bueno aquí hay que decir lo que hay y en ese sentido pues mire fortalecemos aún más el papel

en esta comunidad autónoma la señora gallástegui ha hablado de insistencia sí la verdad que

legislativo normal no lo hice en la ponencia parlamentaria

lógica o normal dentro del procedimiento parlamentario

la regulación se rebajó de legal a administrativa a reglamentaria y no lo hago ahora porque han votado una transacción quitando eso de encima porque a ustedes parece que no les gusta pero bueno yo lo que lo hago es para influir

que es importante lo que yo defiendo que es importante porque tanto la universidad de deusto o las diócesis tienen mucho que decir nominalmente

el proyecto ley elaborado por el gobierno que en su artículo cuarto hablaba de de manera nominal hablaba de eudel hablaba de la upv

o sea de manera nominal hablaba de colectivos claro que sí que tiene

de manera nominal el gobierno ya tiene intención de hacer propuestas en su decreto el señor

de completar de enriquecer un decreto que está pendiente que efectivamente podría haber estado ya aprobado pero lo estará dentro de poco y

el gobierno le propone que no no vamos a regular esto en esta ley que lo haga el gobierno cuando quiera discrecionalmente pues claro que fue fácil de convencer nunca he visto una enmienda

más clara en el convencimiento de que había que aceptarla sí o sí se rebajaba la discusión del artículo cuatro en la ponencia y se le dejaba al gobierno

en ese sentido es lo que hay no bueno insistencia o yo le pido al señor zupiria que incluya en el decreto

porque son expertos en patrimonio cultural vasco muchas gracias eskerrik asko barrio jauna beste norbaitek parte hartu nahi du elkarrekin podemos

de enmendar a todos los registradores de la propiedad de esta comunidad autónoma señor barrio

de los registradores de la propiedad porque tenemos un listado recibido en este mismo parlamento un listado muy amplio de araba bizkaia y gipuzkoa en el cual se recogen todas las inmatriculaciones hechas por

hombre mal hechas claro mal hechas si nos sirve si nos sirve desde tiempos inmemoriales si por la gracia de dios esto me lo quedo yo que es lo que plantean eso está bien hecho

allá usted usted dé explicaciones pero para nosotros vamos por el hecho de que tenga cabida en una

creo que para nada están bien hechas y mucho menos pregúntaselo los y las

que durante años de generación a generación han estado poniendo pasta han estado financiando ese patrimonio que se ha ido creando

titular de ella y bueno una vez aclarada esta cuestión

saiakera liburuan ere biltzen duena con el título del poemario

trataba de poner un ejemplo de una relación amorosa que puede ser la de madre hijo

amigas amantes lo que sea desde ahí quiso transmitir la idea de que aun cuando el vínculo entre dos personas sea muy intenso

esa idea que en su libro crítica del pensamiento amoroso está muy presente

en una relación amorosa aun sabiendo que es difícil un dilema

eusten diote nolabait egoera honi el mundo se enfrenta a una inminente crisis de cuidados

los recortes en los servicios públicos y los sistemas de protección social y los efectos del cambio climático que amenazan con empeorar la situación y aumentar la carga sobre las personas que asumen el trabajo de cuidados

entre dos mil seis y dos mil dieciocho aumento la proporción de personas con dependencia grave o total que reciben atención contratada de forma particular

a servicios públicos o concertados se incrementa también ligeramente la proporción de quienes no reciben ayuda externa setenta y tres mil hogares vascos realizan gastos

ligados a la dependencia el veintiuno por ciento de estos hogares se han visto obligados a realizar recortes en gastos básicos para poder afrontar esta situación por amor por precariedad por no responder públicamente a la responsabilidad que tenemos

clara desfamiliarización y desmercantilización en dos frases necesitamos un sistema público y digno de cuidados para toda la ciudadanía y condiciones laborales dignas para las personas empleadas en este sistema

el de las mujeres para que puedan decidir si quieren o no quieren cuidar eta gobernu honen merkantilizazio

se nos hace increíble que en un trabajo supuestamente elaborado con expertos y expertas sindicatos patronal no se contemple

es todo el sistema de cuidados y si no lo analizamos de esta manera todo lo que podamos proponer por muy interesante que sea serán parches

porque aunque algunos piensen que el problema está en que las mujeres no hemos elegido la carrera adecuada el programa el problema son el patriarcado y la precariedad por eso pedíamos medidas

que se pusieran en marcha ya llevamos cuatro años hablando de cuidados llevamos cuatro años hablando de las mujeres que se dedican profesional o fuera de su profesión que le dedican su tiempo a esta cuestión

a todos y a todas y esperemos que nos pongamos en marcha y que dentro de cuatro años nadie entienda el libro de poemas de mari luz esteban cuando dice

egun on berriro guztioi bueno lo primero yo tengo que agradecerle a la señora etxebarrieta que haya iniciado su intervención leyendo unos versos

siempre se agradece y además muchas veces décimos muchas cosas

en este atril pero pocas veces tienen tanto sentido como los versos con los que ha comenzado hoy

yendo a la cuestión y a la moción que es lo que nos ocupa desde elkarrekin podemos celebramos que los cuidados están presentes en este pleno

a esta institución estamos trabajando para que los cuidados estén en la agenda política vasca para que ocupen un lugar prioritario en el parlamento en el nuevo estatuto o en los acuerdos presupuestarios y por eso celebramos todas las iniciativas que pongan o que vengan a debatir las políticas que impactan directamente en este ámbito

de la política tradicional en la realidad cotidiana han sido las mujeres

las que durante siglos han realizado todas las tareas que necesitamos las personas para sobrevivir y para vivir con dignidad

entero para mantenerse a flote las necesidades especiales de cuidado de personas dependientes niños niñas adolescentes personas enfermas personas mayores o con diversidad funcional son una preocupación cotidiana para todas las familias porque absolutamente

en algún momento de nuestras vidas necesitamos o vamos a necesitar cuidados y ya es hora de que esa realidad cotidiana se coloque en el centro de las preocupaciones de las instituciones y de quienes toman las decisiones es responsabilidad de todas nosotras y de todos los grupos parlamentarios conocer reconocer esta realidad y proponer soluciones concretas

que miles de familias vascas tienen ya entre manos cada día el debate sobre los cuidados también hay que decir que tiene muchas aristas

porque todas necesitamos de los cuidados y las tareas del hogar pero es un debate especialmente urgente para algunos sectores las mujeres pensionistas por ejemplo que han pasado toda su vida trabajando en los hogares y cuidando hoy siguen cuidando a nietos y a nietas toda

a una seguridad social ciega a esta realidad lo necesario para tener una pensión digna las mujeres que hoy son madres y que tienen que conciliar

una vida laboral exigente y precaria con el cuidado de nuestras hijas e hijos porque en el mercado laboral el mercado laboral

como si no tuviesen ninguna otra responsabilidad y al mismo tiempo

exige a las mujeres dedicación casi plena al cuidado como si no necesitasen un ingreso económico digno propio para sobrevivir y ser autónomas

hijas de padres o madres adultas mayores enfermas o dependientes y que deben conciliar su última etapa en el mercado laboral con el cuidado de sus familias

o de los servicios de ayuda a domicilio que están empleadas en un sector

y mayoritariamente externalizado y privatizado y las mujeres trabajadoras del hogar uno de los eslabones

y que tantos debates nos ha traído en esta cámara no es casualidad que en el mercado laboral los sectores feminizados tengan un reconocimiento simbólico menor

los salarios son más bajos y las condiciones laborales más precarias en comparación con los sectores masculinizados no se puede hablar de acabar con la brecha salarial

y no se puede hablar de alcanzar la igualdad sin mencionar cómo vamos a cambiar nuestra forma de organizar los cuidados porque la organización social y económica actual

no reconocido y no valorado el valor económico del trabajo de cuidados no remunerado que llevan a cabo en todo el mundo las mujeres de quince o más años asciende al menos a diez coma ocho billones de dólares anuales una cifra

de la tecnología estos son un texto literal que se publicaba recientemente

y la crisis global de la desigualdad y en ese mismo informe se afirma

de las cuales el ochenta por ciento son mujeres un trabajo como décimos feminizado

no tiene la protección de un salario mínimo ni de un registro de horario y en euskadi tenemos tendencias similares a los datos que nos ofrece el informe

y por ello hay que continuar trabajando son necesarias medidas

a necesidades inmediatas y también que busquen cambios más de fondo más profundos para no estar eternamente poniendo parches en una cuestión tan importante como es el bienestar de la gente no podemos jugar de ninguna forma

tan importante en la sociedad desde elkarrekin podemos hemos traído medidas propuestas y hemos intentado buscar soluciones a través de varias iniciativas y también hemos puesto sobre la mesa medidas concretas para el corto medio y largo plazo

que hemos presentado hoy en este debate proponemos en ella que se cumpla con el acuerdo alcanzado en pleno sobre los cuidados la sociedad más igualitaria y las herramientas

y que el gobierno vasco realice las campañas para reconocer y visibilizar y por supuesto poner en valor los cuidados y su contribución al desarrollo de euskadi

tenemos que reconocer públicamente los cuidados como bien común indispensable para el sostenimiento de la vida reconocer la centralidad del trabajo del hogar y de los cuidados y el rol absolutamente imprescindible de las trabajadoras de hogar su contribución al desarrollo social y económico y así como su bienestar a las personas en euskadi y proponemos una vez más que el gobierno vasco realice cambios normativos y de gestión en todos

especialmente en aquellos relacionados con la contratación y externalización de servicios adoptando medidas orientadas a eliminar

y a garantizar en sus ámbitos de competencia condiciones laborales iguales para las mujeres en trabajos comparables

porque esto es importante destinando para ello la financiación correspondiente lo que no podemos hacer es tener espíritus intenciones muy buenas pero luego no dotar de los recursos suficientes para poner en marcha las medidas concretas que respondan a una necesidad que estamos de acuerdo y que es importante solucionar y también nos parece importante que se incorpore a las trabajadoras del hogar a la estrategia y al plan operativo de acción

entendemos que se ha de contar con la participación y aportaciones

de los agente sociales y económicos y de las personas expertas y del movimiento

uno de los últimos puntos que incluíamos en nuestra enmienda era para recordar que desde nuestro grupo estaremos vigilantes y esta institución debe estarlo

y en los términos acordados el plan elkarrekin zaintzen

que habla de otra forma de organizar socialmente el cuidado desde un punto de vista transformador
y corresponsable entre el estado el mercado las familias y la sociedad civil mila esker eskerrik asko

alderdi popularrak ildo horretatik dagokion jarraipena egingo du como decía volvemos a tratar el tema de los cuidados en este parlamento el tema de los cuidados a la dependencia y

un texto a propósito del debate que se sustanció en relación al decreto de los centros residenciales en la comunidad autónoma del país vasco

dos párrafos de la enmienda de totalidad del grupo popular que instaban al gobierno vasco a revisar dicho

que entendíamos que dicho decreto adolecía de muchas cuestiones importantes

entendido que ese decreto llegaba tarde en esta cámara habíamos instado a este gobierno a remitir

ocasiones y que había que además adaptarlo a la situación actual de los centros residenciales a los diferentes tipos de centros residenciales a la necesidad

mayores pero sobre todo en ese momento pues dijimos que el gobierno vasco

los deberes en relación a esta cuestión dado que ellos mismos habían desoído algunas de las indicaciones que se habían recogido en algunos de los informes que ellos mismos

por eso me ha parecido oportuno a la hora de presentar varios puntos a la moción presentada por euskal herria bildu recuperar

a que haga cumplimiento a la revisión de este acuerdo

dutela arazo honi aurre egiteko eta bereziki behar den arreta eskaintzeko el tema de los cuidados para este grupo para el grupo popular es un tema importante sobre todo también teniendo en cuenta y esta parlamentaria lo ha reiterado en esta tribuna en varias ocasiones que es un sector claramente feminizado

sin duda en el reconocimiento social de la labor que principalmente realizamos las mujeres porque somos principalmente las mujeres las que nos dedicamos a las labores de cuidados que sin duda hay que incidir en cuestiones como son la corresponsabilidad la división de tareas en el hogar

con el cuidado de personas dependientes y sin duda una cuestión en la que también hay que reparar es en el ámbito empresarial y desde luego el gobierno vasco pues tiene que arbitrar las medidas necesarias para que las

necesarios para facilitar medidas de conciliación cuando hablamos de cuidados hablamos de cuidados impartidos por personas

que los imparten que los dan personas que no son profesionales y como tales que no reciben muchas veces una remuneración

que se producen en el entorno familiar en el entorno afectivo

que estos cuidados también son muy importantes algunas veces se realizan por personas que puedan ser profesionales pero otras

personas profesionales y por lo tanto sí que entendemos que este ámbito específico de los cuidados los cuidados que se producen en el entorno

una preferencia para la actuación de cualquier gobierno y en este caso del gobierno vasco puesto que también es el entorno familiar en el propio domicilio

consideran y tienen el deseo de ser cuidadas por lo tanto creo que hay que garantizar sin duda esos cuidados de calidad en el entorno

profesionales y además creo que este tema debe de estar sin duda en la agenda

teniendo en cuenta que la sociedad vasca es una de las sociedades más envejecidas comparativamente no solo con el resto de españa sino con el resto de países

y también teniendo en cuenta el impacto que tiene una sociedad envejecida el envejecimiento de nuestra población en el sistema

de actuaciones en estos dos ámbitos cada vez tenemos enfermos con más enfermedades

con varias patologías lo que se denomina enfermos pluripatológicos y estos enfermos necesitan estos pacientes cuidados en el ámbito sanitario pero también en el ámbito social que es también lo que se conoce como en el ámbito del espacio socio sanitario

izateko como decía satisfacción porque bueno se han recogido todas las propuestas que planteábamos

por el grupo popular en este acuerdo nosotros hablábamos de dar cumplimiento a la moción que anteriormente he señalado relativa al decreto

y también instamos a dar cumplimiento a una proposición de ley también relativa a la presentación por parte de emakunde de un plan integral de acción para analizar la situación y dignificar las condiciones de vida de las mujeres pensionistas vascas

fue por unanimidad lo apoyamos todos los grupos en aquel debate y por otra parte nos parece importante y dado que la consejera también en la respuesta

de personas cuidadoras no profesionales nosotros entendemos que dicha estrategia se tiene que elaborar y remitir a la cámara a la mayor brevedad posible obviamente

pero en cualquier caso creo que este gobierno no puede estar parado que este es un tema absolutamente prioritario es un compromiso del gobierno y por lo tanto pedimos

estrategia a la mayor brevedad posible bueno ya voy a acabar pero

y obviamente al final de la legislatura un paso importante

de los cuidados a favor de que se dé se proporcionen unos cuidados de calidad y sobre todo ponemos deberes

impulse y ponga en marcha aquellas medidas que sean necesarias para que se den unos cuidados de calidad

debatir hoy de nuevo sobre el ámbito de los cuidados y por supuesto lo haremos encantados todas las veces que haga falta pero no es la primera vez que hemos debatido sobre el ámbito de cuidados dentro de esta legislatura recientemente últimamente el catorce de noviembre del año pasado debatimos

sobre presentada por el grupo elkarrekin podemos relativa al plan de choque

del año pasado una moción de elkarrekin podemos referente a mejoras de las condiciones de vida de la ciudadanía

socialista vasco y unos días antes el veinticuatro de octubre del dos mil diecinueve una moción de

relativa al decreto ciento veintiséis de centros residenciales para personas mayores en la comunidad autónoma vasca en todos estos debates en lo que todos los grupos parlamentarios de esta cámara estamos de acuerdo es en la importancia que tienen los cuidados en el desarrollo de nuestra sociedad pero estos cuidados siguen recayendo todavía mayoritariamente

seguir avanzando en la corresponsabilidad de la pareja así como también es necesario contar con una estructura de apoyo institucional que

en caso de necesidad debemos de conseguir con las políticas públicas que se lleven a efecto que la mujer no tenga que renunciar a su carrera profesional por las limitaciones que se derivan de tener que hacer frente a los cuidados necesarios

respecto a hijos mayores dependientes etcétera y además que una persona dependiente pueda elegir si prefiere quedarse en su entorno

otra opción y para ello se deben de reforzar los programas de apoyo en los cuidados garantizando la calidad de los mismos es por ello y por lo que conocedor de la importancia que ello tiene en nuestra sociedad

medidas con el fin de favorecer la conciliación laboral y familiar

en el acuerdo de gobierno firmado entre el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista al principio de la legislatura dentro de estas medidas están la de recoger dentro del séptimo plan de igualdad de mujeres y hombres

de atención a los cuidados hace referencia a ello el gobierno vasco aprobó la estrategia y plan operativo para reducir la brecha salarial en euskadi

y está teniendo importantes resultados también hemos contado con el plan de apoyo a las familias y entre esas medidas hay que destacar la aprobación de una

y está próximo a presentarse la estrategia para personas cuidadoras en breve dentro del plazo previsto para ello dentro de este año

con personas del sector para dar un enfoque transformador de los cuidados y se han adoptado medidas para luchar contra la brecha salarial

no se ha reconocido el valor de este plan operativo para reducir la brecha salarial iniciado a finales del dos mil dieciocho y se ha solicitado varias veces que se realice un nuevo plan a pesar de los buenos resultados que se están obteniendo y en esta iniciativa tampoco y se solicita otra vez

subplanes dentro del plan general para determinados sectores con todas las medidas adoptadas se pretende reforzar el cuidado profesional institucional el cuidado no profesional en la actual iniciativa el grupo proponente solicita la revisión del decreto ciento veintiséis barra dos mil diecinueve

en la moción del veintiocho de octubre del año pasado y tanto en nuestra enmienda a la totalidad presentada

como en la enmienda transaccional nosotros recogíamos evidentemente como no podía ser de otra manera estar de acuerdo en dar cumplimiento

a ese acuerdo adoptado ese día también solicita en el punto segundo

a la presentación por parte de emakunde de un plan integral de acción para analizar la situación y dignificar las condiciones de vida de las mujeres pensionistas y también con eso estábamos de acuerdo tanto en la enmienda a la totalidad presentada por nosotros como en la enmienda transaccional firmado también estamos en esa línea pero de repente lo que me sorprende es que dentro de la iniciativa original se inventan la creación de un fondo

para mujeres que han trabajado durante años en el sector de los cuidados hombre los fondos de compensación se suelen crear normalmente como abono

laboral pero en este caso se supone que lo que se pretende

es compensar retributivamente por parte del gobierno vasco a mujeres que hayan trabajado en el sector de los cuidados eso sí sin aclarar ni qué se pretende ni cómo ni por qué ni qué cuantías se quieren nada de nada de nada

en una anterior iniciativa se pedía que se pagara con efectos retroactivos abonos de cotizaciones a seguridad social a personas que hayan prestado servicios como empleadas de hogar por encima de las cuantías señaladas en la normativa vigente y en esta ocasión lo que se hace es pedir una compensación económica eso sí

con efectos retroactivos también a las mujeres que se hayan dedicado a los cuidados y la iniciativa no tiene ninguna lógica en el punto tercero mezcla con el fin de incluirse dentro del plan operativo para reducir la brecha salarial las personas empleadas de hogar trabajadores

o de los cuidados a nuestro juicio dentro del plan se incluye ya cualquier actividad que pueda estar afectada por esa brecha salarial no hace falta el tener que recoger dentro del mismo subsectores porque ese plan va dirigido a y enfocado a llegar a todos los sectores que pueden que estar afectados por esa brecha salarial

cuando empezamos a intentar llegar a un acuerdo en la enmienda transaccional hubo alguna propuesta por nuestra parte para llevar a cabo esa enmienda me sorprendió que el grupo proponente desde un principio

no voy a intentar el realizar ninguna enmienda transaccional

no veo ningún acercamiento hombre yo creo que posibilidades y muchos puntos de encuentro lo que yo creo que no había era mucha intención visto el primer correo electrónico mandado no había ninguna intención de llegar a ningún tipo de acuerdo

con el grupo popular me sorprende que por ejemplo que

transaccional porque por ejemplo el punto primero que incluimos coincidía con el que ustedes estaban incluyendo y que lo hemos añadido porque nos parecía

añadirlo a pesar de que ustedes no firmaban esa enmienda transaccional

nos parece bastante positivo y completa lo que nosotros hemos recogido

y luego pues la defensa que realizan sobre

se lleve a efecto lo referente a al plan

hombre lógicamente está incluido dentro del acuerdo de presupuestos a mí no me cabe ninguna duda que evidentemente se realizará dentro de los plazos previstos y tal cual se ha acordado por eso también me sorprende que no se hayan sumado porque aunque eso no se recogía eso lógicamente

y yo creo que dentro de nuestra enmienda se recoge esa referencia porque los mimbres que tenemos yo creo que son suficientes los que hay y además tenemos

la estrategia de personas cuidadoras y dentro de nuestra enmienda transaccional se recogía con bastante detalle lo que queríamos recoger dentro

de personas cuidadoras de una forma bastante amplia es por ello por lo que nosotros lógicamente lo que vamos a apoyar es la enmienda transaccional que hemos firmado entre el grupo nacionalista vasco el grupo socialista popular y agradezco el esfuerzo del grupo popular de llegar al acuerdo transaccional que hemos conseguido hoy y siento que grupo de elkarrekin podemos no se haya sumado coincidiendo tanto la enmienda transaccional con lo que

estamos de acuerdo con lo que recogía la enmienda de elkarrekin podemos y así lo hemos trasladado también en nuestra transaccional cuando dice que para avanzar hacia una sociedad basada en la igualdad es imprescindible visibilizar las tareas de cuidados entre otras cosas para reflexionar tanto de los cuidados como de los roles o las funciones asignados a hombres y mujeres entre la ciudadanía

es por ello que instamos al gobierno vasco a que a través de la estrategia de personas cuidadoras impulse un nuevo paradigma con el que poder dar respuesta a una nueva generación de personas cuidadoras

dispuestas a cuidar pero con apoyos reforzando el apoyo los servicios de respiro y apoyo a personas cuidadoras y que promueva la implicación de los hombres en el cuidado

principios debe ser integral y multidimensional y debe tener una perspectiva interinstitucional e interdepartamental

debe incorporar un enfoque innovador que incluya a la propia persona cuidadora como sujeto de derecho debe ser también dirigida a la democratización de los cuidados con una perspectiva de género que sirva para corregir las desigualdades existentes lo veíamos en los datos anteriormente porque es un sector totalmente feminizado

puntu hori nos parece una aportación imprescindible al debate que estamos teniendo hoy especialmente ese tercer punto

bueno pues seguir incidiendo en algunos temas que también

pero como le comentaba a ella desde euskal herria bildu no nos vemos en la disposición por no tener por empezar ni información lo que supone elkarrekin zaintzen no podemos apoyar un plan que no conocemos que no sabemos qué tipo de propuesta supone

que el texto que la propuesta esté encima de la mesa evidentemente cualquier debate sobre esto siempre será bienvenido y podremos aportar algo en torno a eso entonces

por esa razón pediríamos la votación por puntos para poder apoyar todos los puntos salvo este último garrido andreari

podíamos llegar a un acuerdo es que evidentemente no lo veíamos y me parece que algunas veces hay que ser claras y no empezar a

en propuestas y contrapropuestas cuando vemos que el punto de partida no es el mismo nosotras estamos hablando del sistema en general y aquí se estaban

sobre todo el tema de las cuidadoras no profesionales pero bueno dicho esto eta zaintzaz ari garela eta agian ez dakit baina agian

hay un par de cuestiones y hay un par de puntos en los que estamos todas de acuerdo y creo que es un avance y que es importante

con respecto a las políticas de los cuidados ahora bien nosotras recibimos una propuesta de transacción por parte de los grupos que apoyan al gobierno y tal y como le contestamos a la señora ipiñazar nos parecía que esa propuesta

y que de alguna forma no respondía a todas las necesidades y es verdad que ha dicho la señora sánchez que no comprendía el por qué nosotras no nos habíamos sumado a ese acuerdo a mí también me sorprende

que ustedes nos ofrecen una propuesta de transacción que además luego es la que firman con la señora garrido y entiendo que y se lo vuelvo a explicar que para nosotras

de la que dotar a estas medidas que no se veía reflejada en la enmienda y una de las cuestiones que usted decía señora sánchez era la de que no veía necesario

un punto creo que era bastante parecido en una enmienda en la

y la enmienda que proponíamos nosotras en nuestro caso era el punto cuatro y que hablaba de que

en la estrategia y en el plan operativo de acción para reducir la brecha salarial contando con la participación de los diferentes agentes y de asociaciones de trabajadoras usted hablaba de que no era necesario yo le diría que no es que igual no es necesario es que es muy necesario es que además es una cuestión

las propias trabajadas del hogar es que cuando estamos intentando elaborar un plan o una serie de medidas para luchar contra la brecha salarial lo que no podemos dejar de lado y además está muy bien porque ustedes han dicho es que vimos un punto de elkarrekin podemos

y usted me está diciendo que no es necesario visibilizar a las trabajadoras del hogar en el plan

es que lo que no podemos es predicar una cosa pero luego lo concreto en donde tenemos realmente que hacer las cosas no hacerlo y ese es el ejemplo perfecto cuando la estaba escuchando pensaba pues está muy bien estamos todas de acuerdo en que no hay que invisibilizar pero luego a la hora de firmar y de acordar y de tomar medidas

no necesitamos que dentro de ese plan aparezcan específicamente las trabajadoras del hogar y no es una cuestión
entiendo que a nosotras o que a los grupos de la oposición se nos haya isiltasuna mesedez

disculpe se nos haya se nos haya antojado es una cuestión que están pidiendo las trabajadoras del hogar es una cuestión que está ahí y que creo que tenemos que recoger además de todo eso han hablado ustedes

usted ha leído parte del compromiso y del acuerdo y está bien pero yo quería recalcar que para nosotras es que es importante

que ha de llegar y con la que evidentemente estamos de acuerdo

apoya o sea habla de las personas cuidadoras no profesionales es

pero no propone un cambio de paradigma y aborda un ámbito parcial de los cuidados y no de una forma completa

es que abordemos las soluciones desde un consenso que seguramente en intención

su intención porque dentro de la forma de acordar de no acordar o de negociar la verdad que ha sido usted

dicho esto a nosotras sí que nos gustaría también pedir la votación por puntos porque hay cuestiones de la de la moción tanto de evidentemente de la moción que de la enmienda transaccional que presentan los grupos que apoyan al gobierno en las que estamos de acuerdo porque son similares

están se han votado y se han acordado en esta cámara y que por lo tanto sería una incongruencia por parte de cualquier grupo votar en contra de algo que ya

y a partir de ahí nosotras también entendemos que nos gustaría

como la de la moción de la señora etxebarrieta porque hay cuestiones que compartimos en el fondo pero que es verdad que a veces nos falta concreción

y entiendo sus razones y yo le digo que hay cuestiones que usted proponía en su moción que realmente bueno en intención nos parecían a veces un brindis al sol porque estamos de acuerdo pero no concretábamos por lo tanto yo creo que es un buen camino para seguir trabajando esto se lo digo a todas las portavoces de los grupos que han intervenido creo que este es el camino

pero entendiendo que los cuidados han de ser una cuestión central trasversal transformadora y que tenemos que tomar medidas realmente profundas mila esker

bueno voy a ser breve señora etxebarrieta yo

es que habiendo negociado también muchas veces con usted siempre hace

a algún tipo de acuerdo y es que en esta ocasión de repente antes de empezar a hablar entre todos

no voy a hacer ni el más mínimo esfuerzo y entonces sorprende porque entonces

son importantes y esas formas lo que te hacen ver es que no había ninguna intención de intentar llegar a ningún tipo de acuerdo a lo mejor porque estamos

pero es que no he visto ninguna intención de llegar a un acuerdo y luego nosotros no podemos estar

hay algunos puntos como he puesto de manifiesto en mi primera intervención con las que

tanto la enmienda a la totalidad como luego al final la enmienda transaccional que hemos firmado con el grupo popular pero ha recogido cuestiones como la creación del fondo de compensación para todas las personas cuidadoras que hayan trabajado

en esa actividad pues que es un brindis al sol que es una cosa que no tiene

de manifiesto dentro de mi intervención yo creo que estamos

esa es la estrategia de personas cuidadoras ya se anunció se ha anunciado recientemente y además se va a finalizar en breve

se va a presentar y se va a poner en marcha y que implica y que va a implicar un cambio de paradigma importante para nuestra sociedad en ese sentido yo creo que esa es

enmienda transaccional porque nosotros creíamos

especialmente importante a nosotros no nos importa que se vote por puntos pero desde luego nosotros lo que apoyaremos será la totalidad de nuestra enmienda transaccional firmada entre el grupo nacionalista vasco socialistas vascos y el grupo popular nada más

pleno honetara como saben el mapa escolar es un instrumento básico y fundamental para planificar la oferta educativa del país vasco

mapa vinculado al territorio y a la consecución de unos objetivos determinados determinados por la ley

no deberían ser otros que el desarrollo de una educación inclusiva y equitativa en el conjunto de todo el sistema y en todos los pueblos y barrios del país independientemente del código

eskainiko dituztela bermatzeko hain zuzen ere es una herramienta clave para el desarrollo de la educación pública o la continuidad

más peso respecto a la pública la concertada pública tiene un cincuenta con poquito y la concertada un cuarenta y nueve y casi cincuenta por ciento

la cifra de la educación pública es del sesenta y cinco por ciento en iparralde del setenta por ciento en castilla la mancha de casi el noventa por ciento

escolar para adaptarla a la nueva realidad y los cambios previstos para los años que venían

del tema de la tasa de natalidad y la complejidad que tiene ese tema también de la llegada de los nuevos y de las nuevas vecinas a nuestro país

generalizando que el desequilibrio entre las necesidades educativas y las ofertas de plaza también se va acentuando o por ejemplo la evolución de los modelos lingüísticos y que además esto tiene una incidencia especial en la organización de la oferta formativa de los centros públicos de cara al futuro adibidez

nagusi bat y este es su modelo señores y señoras del partido nacionalista vasco

mientras a nivel estatal se reduce y esta segregación socioeconómica es la segunda tasa más alta del estado

pero que la repetición de curso en euskadi es socialmente muy injusta a igual rendimiento

que el de más recursos y esto es una situación que ha ido empeorando desde el año dos mil quince o por ejemplo la diferencia en matemáticas entre el alumnado de origen

de origen nativo crece desde el año dos mil quince y es la más alta de españa y la tercera de la ocde podríamos hablar de más datos y más estadísticas pero en

ez dauka lo que hay de fondo es si asumimos que la escuela pública vasca es el eje de nuestro sistema educativo

seguramente ayer lo estuvimos hablando hay mucho margen de acuerdo en muchos temas educativos

estamos asistiendo a una competición entre colegios para atraer a familias como si fueran ofertas y saldos de supermercado con un añadido

existe también hay competencia desleal pero a favor de la concertada y que esa mano invisible negra que como digo en el mercado no existe

del gobierno del partido nacionalista vasco fomentando la red concertada la gran competencia desleal en la educación en estos momentos decía que

podría haber acuerdo seguro y hemos llegado a acuerdos en educación ayer hacíamos alguna

el acuerdo que tuvimos ayer sobre el profesorado de francés pero hemos tenido más de los que pensamos pero hay razones de fondo que nos separan y una de ellas es la sacrosanta libertad de elección de las familias a la hora de elegir un centro

trabajadoras por ejemplo del barrio de miribilla de bilbao a la hora de elegir un centro

treinta y tres años que tengo nadie me ha convencido de que haya igualdad de oportunidades a la hora de elegir un centro en euskadi si atendemos a criterios de renta

y es una gran mentira este tema de la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a la enseñanza

no les funciona nada mal por desgracia pero es una gran mentira al fin y al cabo

que hay que rediseñar ese mapa escolar de una vez por todas que hemos puesto muchos ejemplos en el día de hoy y a lo largo de estos años en la comisión

realidad que eso ya lo decía como decía antes el decreto del propio gobierno en el año dos mil nueve que tiene que planificar

de matrícula de enseñanza pública sin atender que se reorganicen las zonas escolares con oferta desde los cero años hasta los estudios de bachillerato incluyendo también los ciclos

ezberdinekin adostasuna behar dugu zentzu horretan pensamos que hay que prestar especial atención en el rediseño de las zonas con valores bajos

lingüístico es decir discriminación positiva discriminación positiva necesitamos dar más a los que menos tienen para que alcancen los

alcanzan los que más tienen y no de forma parcial sino rediseñando el mapa escolar en todo nuestro territorio eta esaten nuen bezala baita ere

sistema nagusiena dos de cada tres alumnos

está en el sistema público yo creo que el último punto hablar yo creo que es fundamental para entender la voluntad y por qué no hemos llegado a un acuerdo en este sentido en este punto y en estos años en la comisión de educación

honekin ez dugu negoziatzen no negociamos para nada con esto es un punto muy claro

que nos perdemos entre decretos órdenes y

la demanda si no somos capaces los cinco grupos parlamentarios de firmar esto es que hay compromisos ciertamente dudosos con el desarrollo de la educación pública mi grupo lo propone lo hemos firmado también

la demanda como pasa como pasa en muchas zonas de nuestro país y como pasa y está estallando en las manos del gobierno pasa en

hemos tenido huelgas en la concertada movilizaciones de la pública falta de acuerdo falta de desarrollo de los acuerdos con los sindicatos de la pública no se ha presentado la famosa ley de educación y si se presenta en los días

abocada al fracaso tiraron una ilp popular una iniciativa legislativa popular a la basura

debate diciendo que bueno que esas medidas las iban a incluir en la ley de educación

perdida en esa materia y además lo más grave no hay confianza entre los interlocutores que tienen en el sistema público ni con los sindicatos ni con las

al frente en la medida de nuestras posibilidades hoy mañana

pública porque utilizando la aportación de un gran intelectual de una persona que se nos acaba

pero solo la educación pública es necesaria eskerrik asko eskerrik asko

decía el proponente que esta es una propuesta del año dieciocho cierto es pero es una propuesta del año dieciocho que si bien no ha sido debatida hasta ahora estos temas los hemos ido debatiendo debatiendo y debatiendo

hemos escuchado aquí cosas con las que creo que yo todo con las que creo yo que todos estamos de acuerdo

con las que no podemos estar de acuerdo ahora a diferencia de lo que hace el proponente que divide el mundo entre buenos y malos y no cómo puede ser que no firmen los cinco grupos estos si no firman es que hay intereses ocultos usted lo ha dicho eh nosotros no queremos eso

entre conmigo contra mí el mundo se compone de seres humanos que intentan llegar a acuerdos entonces vamos a ver

usted habla de rediseñar el mapa escolar para que la enseñanza pública

mire serán palabras pero las palabras son importantes el eje del sistema educativo deben ser

ese debe ser el eje y nosotros en eso creemos firmemente y luego

que puede chocar pero usted hace un antagonismo entre la pública y la concertada y luego dice que hay un cero coma ocho de privadas

no las he encontrado en euskadi dice que hay un ceroocho por ciento de privadas luego en gipuzkoa no hay ninguna pero vayamos a esto

sabe lo que le digo que la escuela concertada también es pública

pero cómo no va a ser la escuela concertada pública si el departamento de interior fija todas las reglas todas

lo supervisa lo controla e incluso

o sea que me va a perdonar pero la escuela concertada también es escuela pública bajo el absoluto control de lo público excepto

porque con el el departamento de educación considera que un niño en la pública cuesta siete mil y pico euros en la privada

cuesta cinco mil y pico euros entonces las dos son públicas lo que pasa es que una está discriminada respecto de la otra eso es lo que nosotros pensamos a ver qué es lo que siguiente que dice usted zonas con valores más bajos indicadores

si vamos a estar de acuerdo mire ustedes se presentan como el adalid de la escuela pública que ya le he dicho que la concertada también es pública pero

pública y se presenta como el adalid su grupo perdón adalides de la pública somos todos y desde luego no va a ser usted

que nosotros no lo va a ser el problema es que ustedes

quién está con la pública sino porque eso la respuesta es unánime todos estamos con la pública

quién quiere exterminar a la concertada y además mire le voy a decir ustedes se refugian en unos fantasmas del pasado que es que son increíbles y que en mi opinión

flaco favor a lo que ustedes llaman exclusivamente escuela pública la presentan como victimizada la presentan como marginada la presentan como discriminada y entonces en realidad están rebajando su valor mire en la escuela pública hay de todo

un poco menos de todo como también en la pública concertada pero

a médicos conozco todo tipo de clase media y algunos incluso con un poder adquisitivo notable porque trabajan son de clase media los dos miembros de la pareja y trabajan y son hogares donde pueden estar entrando

y que llevan a sus hijos a la pública así es que por favor

a la escuela pública poniéndola como si fuera vamos un sitio horrible y miserable no lo que sí hay es centros

que necesitan muchísima ayuda sobre todo en temas de infraestructuras en temas de infraestructuras ya a nivel general en temas de profesorado porque quiero recordarle que ayer mismo oímos cómo un colegio que está haciendo un esfuerzo un colegio público

resulta que el año que viene el noventa por ciento del profesorado va a ser nuevo eso sí es un problema pero no me describa la escuela pública como lo peor de lo peor porque hay de todo y mire le voy a poner un ejemplo usted nos ha dicho castilla y león y nos ha dicho que el noventa por ciento de castilla y león

y tiene unos resultados maravillosos el problema de la escuela pública es la calidad la calidad y es lo que tenemos que perseguir

una mejora radical de las infraestructuras y necesitan que estos años tan malos para el profesorado porque hay tantas jubilaciones por muchos motivos pase cuanto antes y voy a dar este pleno un dato que nos dieron en una comisión anterior pero creo que debiera ser del conocimiento de todos los parlamentarios que a mí me puso los pelos de punta

que por cada tres profesores por debajo de los cincuenta hay diecisiete profesores por encima de los cincuenta

qué futuro humano tenemos tres profesores por debajo de cincuenta

alrededor de los cuarenta por diecisiete por encima de los cincuenta todo eso

y nos van a tener ustedes a su lado para arreglarlo pero claro lo que no se puede hacer es dividir el mundo entre

de dónde sale la concertada bueno yo no sé pero este país tiene tradiciones tiene tradiciones largamente honradas y una tradición ha sido

se formaran bajo una perspectiva de cristianismo humanista por qué no

de considerar que el euskera era una herramienta que había que trabajar y que era de las cosas más importantes en la educación por qué no pues tenemos las ikastolas también hay

que también honran una tradición muy larga de este país que deciden autoorganizarse de dónde salieron aquí si no las cooperativas

el de la autoorganización y decidieron autoorganizar

bajo la forma de cooperativas por qué no por qué no eso es lo que da a nuestra sociedad la pluralidad

para mí lo contrario de discriminación sabe lo que es lo contrario de discriminación es igualdad en derechos y obligaciones

elegir dentro de las posibilidades que ofrece la ley porque el que no pueda elegir dentro de las posibilidades está discriminado

pero yo creo que para ustedes lo opuesto a la discriminación es la uniformidad es la uniformidad

oído a la proponente en el punto anterior a la señora etxebarrieta que ha estado tan poética me ha gustado mucho su primera intervención

se me ha ocurrido un símil yo creo que ustedes entienden

donde todos somos ovejas que necesitamos perro guardianes alrededor moviéndonos los tobillos bajo una especie de profeta

que nos dice cuándo comer dónde ir cómo hacer

esa figura me ha venido oyéndole a la señora etxebarrieta no es que sea poética como la entonces favor respetemos la pluralidad del país respetemos las tradiciones del país y volquémonos volquémonos

el sistema educativo y sobre todo los tiene más

del departamento de educación muchos colegios públicos hay algunos fantásticos y que funcionan muy bien e intentemos elevar el nivel de calidad en fin

hoy debatimos una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario elkarrekin podemos relativa a la revisión y mejora del actual mapa escolar y su adecuación a la nueva realidad y según la ha presentado el

le parece una discusión troncal fundamental y esencial para el futuro de la educación por eso llama tanto la atención que haya estado en un cajón desde el año dos mil dieciocho sin que ese tema tan absolutamente trascendental importantísimo y crucial

no haya tenido ocasión en estos casi dos años de traerla a discusión de este parlamento pero en fin no lo critico solo lo señalo y efectivamente

de una forma rigurosa y detallada atendiendo a los tres territorios vascos y sus municipios para por un lado garantizar una oferta

continuada sobre todo atendiendo al modelo lingüístico que principalmente se da entre la educación secundaria obligatoria y el bachillerato además esto ha sido cuestión de debate ya en algunos municipios como por ejemplo en barakaldo y por otro atendiendo también a unos determinados inputs como son el demográfico el geográfico el social el cultural

se trata de hablar de la ordenación y planificación para realizar un análisis exhaustivo de la situación y que esa garantía de oferta completa en cada territorio sea real los socialistas así lo entendemos y así debe de ser el mapa escolar tiene que ajustarse a la realidad existente

atendiendo diversos factores como los que he mencionado

satisfacer las necesidades educativas del país y asegurar la cobertura de las necesidades educativas y creemos sinceramente que esto el gobierno lo tiene en cuenta porque es competencia del departamento de educación que es quien tiene la potestad de planificar pero desde luego eso no quita para que haya que darle una repensada al mismo

para adaptarlo a las necesidades y a la realidad actual que como todas las realidades vivas es cambiante porque es cierto que las sociedades avanzan cambian

tiene que ir de la mano con la actualización con una adaptación en definitiva a la realidad porque es cuestión de eso de adaptación conforme a la realidad social y demográfica

esta es la clave en este debate atender a la demanda de matriculaciones la oferta de plazas los modelos lingüísticos teniendo a la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo que es como siempre

los socialistas la planificación de la oferta educativa en nuestra sociedad

su configuración a través de los mecanismos establecidos para ello son la manera democrática probablemente la única de gestionar el derecho universal de la educación en nuestro país y se debe asegurar una educación que garantice la igualdad de oportunidades que no existan desigualdades en los centros educativos y entre los centros educativos entre sí

a sus alumnos y que segreguen al mismo aunque es cierto que se dan en ocasiones esas circunstancias y eso origina desigualdades y diferentes velocidades educativas

los obstáculos socioeconómicos y que garantice la cohesión de la sociedad incidiendo hasta en lo más sectorial como que barrios no se queden aislados y sin oferta educativa

que atienda a los alumnos y alumnas con necesidades especiales de todo esto hemos tenido oportunidad a lo largo de estos años de debatir largo y tendido en la comisión de educación

de nuestros alumnos y alumnas de nuestros vecinos del futuro del país

la misma preocupación esto es un trabajo conjunto en el que evidentemente la competencia es del departamento pero en todo caso tenemos que garantizar un sistema educativo de calidad y que garantice y promueva la igualdad de oportunidades yo me voy a quedar con ese llamamiento

invocando a un esfuerzo compartido en el que hay que establecer esfuerzos evidentemente cesiones mutuas

en el que la educación tenga la estabilidad y la solvencia necesaria para no estar sujetos permanentemente a los cambios políticos como por desgracia viene ocurriendo

pero en fin señor martínez sabemos que estamos en un momento en el que se especula que es un momento electoral y usted ha hecho una intervención que evidentemente

llevarlo hoy hasta la intervención que usted ha tenido porque si realmente como le decía al principio esto era un tema tan absolutamente importante y troncal no acabo de entender por qué en todo el dos mil dieciocho ni en el dos mil diecinueve ha habido tiempo ni ocasión ni oportunidad para plantear aquí este debate no y yo le entiendo y no lo critico es legítimo en fin ante una posible

hacerlo a través de la educación y lo significo porque no es baladí es cierto se hace por ese motivo fundamental es legítimo

volver a lo que debe ser la educación en este caso no solo con este tema con todos

la educación el derecho a la educación para que esto sea factible para que sea viable para que sea realmente de calidad de excelencia educativa

político de ponerse de acuerdo en la definición del marco educativo que queremos para euskadi y eso significa que todos tenemos que dejar en la gatera alguna cuestión

lo creemos firmemente desde el partido socialista para lograr la articulación de un modelo educativo que dé satisfacción a las demandas reales no a las inventadas que también las hay por desgracia a las demandas reales de la sociedad y ese es el enorme trabajo y el enorme reto que tiene este país

la calidad democrática de los vascos durante mucho tiempo es verdad y yo lo reconozco que el hecho de que exista un reparto de redes de al cincuenta por ciento

donde existen países donde incluso el cien por ciento de la educación está en manos exclusivamente públicas esa realidad a nosotros tampoco nos gusta

creo que esta realidad hay que cambiarla de forma gradual y paulatina si no no será posible hacer el cambio creo que eso lo tenemos que tener todos en la cabeza y de hecho hemos estado a punto de poder firmar con ustedes una enmienda transaccional en el que había un amplísimo territorio común donde se compartía qué ocurre que ustedes querían marcar una oposición política yo lo entiendo

pero yo quiero quedarme con el otro noventa por ciento que hubiera sido perfectamente posible firmar con ustedes y con algún otro grupo parlamentario también

porque existe ahora mismo una normativa legal en marcha que impide hacer ya mismo lo que usted plantea pero sí se puede plantear la modificación gradual de esa situación para llegar a una situación mejor que la existente creo que ese es el camino nosotros vamos a apostar por él

que no haya sido posible alcanzar con ustedes un amplio acuerdo en esta materia eskerrik asko pastor jauna

esta iniciativa tiene que ver con las campañas de matriculación y que mañana termina el plazo de matrícula pero esta iniciativa

congelador por lo que entiendo sobre todo a la hora de ver la presentación de la iniciativa que esto tiene algo que ver con algún otro tipo

horiei buruz no lo comparto pero puedo llegar a entender que ustedes consideren que no les conviene llegar a acuerdos con los grupos que sustenten al gobierno en estos momentos es legítimo pero me parece irresponsable utilizar argumentos como los que han esgrimido una vez más en esta tribuna para abonar el campo del enfrentamiento entre redes educativas y me parece irresponsable dar a entender

cuando la realidad es que vive en un permanente proceso de adaptación y adecuación y como me parece irresponsable por eso mismo no voy a entrar en ese juego de enfrentamiento porque nuestro grupo

redes así como a generar enfrentamiento dentro de cada una de las redes educativas en lugar de favorecer la colaboración y la cooperación

la enmienda que presentamos hace dos años pivotaba sobre cuatro ejes que eran la garantía de cohesión la adaptación del mapa escolar

y entendemos que esa enmienda sigue siendo absolutamente válida a día de hoy talde proposatzailearekin erdibideko bat lortzeko ahalegina egin dugu baina ez da posible izan

berritzaile bat eta komunitario bat baita ere garatzeko y señora bengoechea nada más lejos del discurso que ha realizado usted ha sido mi intervención es cierto que mi horizonte ideal y el de mi grupo parlamentario es una defensa

cuanto más desarrollo más si quieren hablar en términos de porcentaje tenga mucho mejor pero totalmente alejado de la uniformidad

que hacer pero garantizar la libertad de elección no solo ponerlo

pensamos y lejos totalmente lejos y vuelvo a revindicar en este y en otro debate que cuando se hace una crítica de algo que pensamos que funciona bien funciona regular o funciona

lo contrario es la misma matraca que sufren sindicatos y es la misma de matraca que sufren también

todo lo contrario son críticas para construir una escuela pública muchísimo mejor de la que vuelvo a decir le invito a leer cuando quiera la intervención he dicho que tenemos también tiene muchos problemas claro que sí y entre todos tenemos que superarlo y señor pastor

pero no no es verdad lejos de intereses electorales es cierto que la oportunidad

esta semana tiene mucho que ver con la campaña de matriculación obvio pero

de esos intereses electorales con el fondo de su discurso yo creo

un acuerdo usted y yo nuestros grupos parlamentarios aquí en madrid que dice bastantes cosas interesantes para la educación y mi compromiso mutuo espero es con ese cumplimiento y de hecho si eso se desarrolla como esa derogación de la lomce y sobre todo los aspectos más lesivos

representa al partido que desarrolló

un campo de juego y espero que la siguiente legislatura en euskadi también vaya por esos derroteros por ese acuerdo de gobierno que ha habido

educativa esa prohibición de la segregación por sexo que por desgracia aunque sea minoritariamente se repite en euskadi eta

muy lejos del enfrentamiento muy lejos del enfrentamiento o sea creo que

ha demostrado en esta legislatura en educación y en otras materias ha sido capacidad de acuerdo y en este país muchos más y recientemente por ejemplo en irún en los acuerdos presupuestarios un acuerdo transversal desde la izquierda en irún eso no es acordar por ejemplo acordar solo es cuando acordamos con ustedes o el gobierno del estado que citaba

hace poco yo creo que capacidad de acuerdo capacidad de negociación capacidad de llegar a acuerdos en materia educativa sí pero

que mientras haya plazas públicas suficientes se concierte un solo aula más en euskadi y eso es lo que ha pasado más de una vez en estos cuatro años y no

bueno vamos a ver tanto el representante de elkarrekin podemos como la representante de euskal herria bildu

ustedes saben que por lo menos con nuestro grupo pocas veces hemos dejado en la estacada a alguien

asociaciones de padres y madres sean los grupos de especialistas en necesidades especiales de apoyo sean

nos tocó el corazón y creo que mis palabras fueron bien claras de apoyo por cierto con ese programa tan bueno que tienen de lagun berriak que me dejó francamente

pero lo que yo vuelvo a decirles es que hay diversidad miren el año pasado en la campaña para matricularse

que más o menos es el de este año se anunciaba con muchos colorines y desde luego era muy alegre y muy esto y además ya les dije que salía mi nieta o

pero vamos a ver se anunciaba la escuela pública como laica como laica y como euskalduna vamos a ver

ez da porque si alguien quiere que sus hijos se eduquen en un ambiente donde impere el humanismo cristiano ez da

la escuela pública ahí no satisface una aspiración legítima de los niños y euskalduna bueno y si un padre quiere ir al modelo b

la señora ubera nos ha hablado de distintos municipios y aquí está saliendo uno que ella no ha tocado que es oyón oyón oyón el problema de oyón vamos a ver el problema de oyón es que en oyón

nunca y les voy a decir una cosa y aquí prepárense para rasgarse todas las vestiduras

pero también hay derecho a no saber euskera también lo hay

no es que vaya a la concertada cuando no cabe en la concertada se pasa ni medio kilómetro y se va a logroño a estudiar y entonces claro ustedes quieren poner

ahí un centro público en modelo quinientos y los de oyón pues lo siento mucho pero es que

está yo creo en la historia no creo que podamos ir para atrás para atrás para atrás hasta un momento

esas personas hablarán en euskera y eso es lo que pasa en oyón porque hay derecho a saber euskera claro que sí pero también hay derecho a no saberlo

cuando nos encontramos con toda esta diversidad con toda esta diversidad tenemos que entender que tiene que haber distintas

formas de enseñanza distintas formas de enseñar a ver qué más tengo aquí apuntado bueno luego hay otra cosa ustedes hablan de

miren yo tengo ahora en la cabeza el caso de una niña pakistaní que le ha tocado ir le han puesto

a un centro concertado le ha mandado el organismo ese

están deseando que llegue el año que viene para hacer el traslado de matrícula

traslado de matrícula y es absolutamente humano que grupos que tienen circunstancias parecidas quieran estar juntos entonces usted tendrá que zonas donde hay

por mucho que usted meta a esos niños en la concertada

que encuentran culturalmente más afines lo mismo con personas que vienen de sudamérica con mismo de personas que vienen del magreb con mismo personas que vienen

calidad en cualquiera que sea el centro del que estemos hablando y toda la ayuda vamos toda la ayuda no toda la exigencia al gobierno que para eso estamos para que arregle algunas infraestructuras que la verdad es que están penosas

con el problema de los profesores para que puedan estar en sitios donde tengan una vida laboral de quince veinte años en todo eso nos van a tener con ustedes pero primero la

de darles a sus hijos aquello que consideren más adecuado

de su grupo parlamentario ha posibilitado con su

destinados a becas no universitarias a usted le parece que eso no es seguir impulsando un sistema educativo que contribuya a superar los obstáculos socioeconómicos garantizando la cohesión

a diferencia de lo que piensan y manifiestan ustedes mire por dónde yo sí creo que el entonces consejero tontxu campos miembro de su coalición

adecuado y que ejerciendo con responsabilidad la administración debe seguir esos principios a la hora de rediseñar continuamente el mapa

he de reconocer que la enmienda que han firmado ustedes me parece francamente innovadora en lugar de fusionar la iniciativa de elkarrekin podemos con la enmienda presentada por la señora

ustedes han hecho un mix entre la iniciativa de elkarrekin podemos y una iniciativa de eh bildu de dos mil veinte que curiosamente fue rechazada su acumulación por parte de elkarrekin podemos por tanto digo yo que a la señora ubera le debía parecer floja la posición de eh bildu dos mil dieciocho o no apropiada

por tanto me parece innovadora su enmienda de transacción

por una propuesta de adaptación del mapa escolar en bilbao concretamente el barrio de santutxu y lo publicó uno de los padres intelectuales de aquella ilp que mencionaba el señor martínez que tanto les gustó a ustedes y que iba a ser el bálsamo

después de hacer algunas reflexiones sobre el trasfondo de las posiciones de los diferentes colectivos implicados en el conflicto así como de algunos pronunciamientos de ustedes de elkarrekin podemos y de eh bildu

a la administración no se le puede pedir que sea audaz en su planificación para tomar medidas contra la segregación y criticarle cuando lo hace hagamos pedagogía para superar los miedos sociales

una oportunidad sí pero al mestizaje y a la convivencia y no le hagamos la vida imposible a la administración cuando hace los deberes espero que sigan ustedes a este autor con el mismo

gracias señora presidenta señor lehendakari consejeros señorías

desde el grupo popular ante este pleno hace referencia al consejo regulador de la denominación de origen calificada rioja concretamente a la representación de las instituciones competentes en los órganos de gobierno de este consejo que son el pleno y las comisiones de trabajo

navarra rioja y país vasco y dentro del país vasco es la comarca de rioja alavesa

la que comparte esta denominación de origen calificada rioja dos notas singulares de esta denominación

nuevas formas de producir el vino el vino riojano se dota de identidad propia vincula el nombre a su origen y los productores viticultores y elaboradores sienten la necesidad de proteger la identidad de sus vinos usurpadores y falsificadores y de ahí surge su reconocimiento oficial el seis de junio de mil novecientos veinticinco la denominación de origen rioja la más antigua de españa la primera que pronto cumplirá un siglo y además en mil novecientos noventa y uno se convierte en calificada

solo estas dos denominaciones tienen al día de hoy este valor superior de calificadas dentro de las setenta denominaciones de origen de españa por lo tanto

la primera de españa y calificada el consejo regulador es el órgano de gestión de la denominación de origen vigila audita y controla todo el proceso de elaboración del rioja desde la viña al mercado

de añadas el trabajo de inspección todo lo necesario para garantizar el origen la añada el tipo de elaboración y el control también en la fase

en el pleno del consejo máximo órgano de gestión se marca la política de la denominación por un lado está el desarrollo y el control productivo

esto que radica su competencia en nuestra comunidad autónoma en la diputación foral de álava y luego la promoción y la orientación a los mercados

sectoriales bodegas y viticultores y también participan con voz y sin voto el representante del ministerio y los representantes de las tres comunidades autónomas

en el país vasco la ley de relaciones entre las instituciones comunes de la comunidad autónoma y de los órganos forales de sus territorios fija las competencias de los territorios y así en el artículo zazpibuno especifica que la viticultura y la enología son competencia de los territorios la diputación foral de álava en este caso ejerce la competencia en estas cuestiones de forma habitual con la única excepción del consejo regulador

desde el grupo popular no es la primera vez que planteamos esta cuestión y ya en dos mil cuatro desde el gobierno popular de la diputación foral de álava se planteó

la necesidad de participar en el consejo regulador y es verdad

para una cuestión que afectaba directamente a la producción y acudió a ese consejo

álava está limitada en sus competencias en el consejo regulador pero no solo el grupo popular pensó y manifestó esta limitación sino que en enero de dos mil diez

el grupo nacionalistas vascos presentaba en esta cámara una proposición no de ley donde instaba al gobierno vasco a que en aplicación del principio de

transfiera o comparta la representación de la comunidad autónoma vasca en el consejo regulador de la denominación de origen rioja a la diputación foral de álava no pedía el voto pedía que se transfiera o comparta la representación en aquel momento se aprobó por unanimidad en esta cámara

denominación de origen calificada rioja se comparta con la diputación foral de álava así se recoge en el acta de la comisión

y lo que habíamos aprobado en su día en esta cámara la realidad es que el gobierno vasco la viceconsejeria de agricultura ha perdido interés por participar en este consejo no acude con regularidad lleva dos años casi sin asistencia del viceconsejero de vez en cuando ha ido algún técnico el último año prácticamente no han acudido es lo que nos ha animado a presentar esta iniciativa

sea importante cuidar mimar y estar expectante a todo lo que rodea a la denominación de origen calificada rioja hablamos de una comarca con

donde el vino de rioja es el motor económico de la zona y que genera en torno a veinticinco mil puestos de trabajo directos e indirectos nosotros planteábamos una

sencilla y clara decíamos como se dijo en aquel momento en esta cámara que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a delegar la representación ante el consejo regulador

cuando se traten asuntos de competencia vitícola y enológica

esta cámara pero como no se cumple insistimos en la necesidad de que esto sea así por el bien de la denominación por el bien de los viticultores por el bien de las bodegas de rioja alavesa las enmiendas que se nos han propuesto a los grupos el gobierno el pnv el grupo socialista dicen que

origen calificada rioja para que las comunidades autónomas participen con voz y voto en los plenos y en las comisiones del consejo y que se cumpla la participación

y que se aplique la participación en ambos órganos o que se incorpore a la participación en ambos órganos a la diputación foral de álava

nunca nunca hayan pedido el voto en el consejo cuarenta años y nunca han pedido han sentido esta necesidad de votar

y otra cosa aquí el gobierno vasco participa en los consejos reguladores de las denominaciones de origen de txakoli y tampoco tienen voto no tienen voto tampoco lo han pedido tampoco manifiestan el interés por ello y además hacen una cosa especial en la enmienda piden para el país vasco dos representantes el del gobierno vasco y el de la diputación no piden que uno acuda a

no piden dos cuando solo puede ser un representante

es competencia de cada comunidad autónoma determinar quién ha de ostentar su representación es una competencia del gobierno vasco determinar la representación de la diputación

no puede acudir al consejo porque el gobierno vasco no lo quiere determinar así esto es lo que hay lo que tenemos no hay que desviar balones fuera señorías del gobierno entiendo que su criterio no tiene coherencia y que muestra un gran desprecio por el consejo cuando

tampoco propicia que acuda la diputación foral de álava como administración competente señorías no podemos tener en cuenta su iniciativa nos parece

patada para arriba que el ministerio decida y eso sí que nos

ayuda a pensar que el interés suyo por la denominación de origen rioja no tiene nada que ver con lo que se debate en el consejo con la producción con la comercialización

no en la producción de rioja en álava en este caso y la denominación elkarrekin podemos pues ha presentado una enmienda que nos parece bueno que en definitiva habla

pero lo que falta es determinar si realmente que debe de participar la diputación

el eje central de la polémica en este caso y de la falta de participación porque es muy importante participar en ese consejo regulador ahí se deciden todas las medidas para

pliegos de condiciones de la denominación de origen y la administración competente lógicamente tiene que formar parte de ese consejo es obligado que forme parte

la idea es buena pero no completa con el origen de la iniciativa en cuanto a la iniciativa de eh bildu bueno pues decir que

que la competencia para decir y determinar quién debe estar representando en el consejo regulador pues lo tiene que hacer la comunidad autónoma vasca y si

mucho nos tememos que vista la enmienda y sabiendo

por lo tanto esta es la iniciativa que ponemos sobre la mesa y

bueno pues ustedes son libres de apoyar esta iniciativa o no muchas gracias

hay un viejo dicho castellano que dice aquello de reunión de pastores oveja muerta y en torno al vino al vino de la rioja o al vino de la rioja alavesa la verdad es que hay mucho pastor hay muchos intereses intereses económicos

intereses particulares todos ellos que muchas veces no van en consonancia con el que debería de ser el bien común de la comarca y si bien es verdad que el vino no es una oveja muerta el vino no está muerto y tampoco se puede decir que sea un sector agonizante sí es verdad que tiene problemas sin resolver y que tiene retos a futuro retos a futuro tan importantes como

como los aranceles a las exportaciones no solo a estados unidos

se impondrán aranceles retos como la pervivencia de pequeñas bodegas familiares como el relevo generacional o incluso por qué no el despoblamiento rural en ciertos núcleos y en torno a esta oveja

el vino de rioja alavesa hay muchos pastores hay muchos pastores está el gobierno vasco está la diputación foral de álava está el consejo de la denominación de origen rioja están nuestras entidades locales la cuadrilla de rioja alavesa y los ayuntamientos están las grandes bodegas y están también las pequeñas bodegas

agricultores y agricultoras y también trabajadores y trabajadoras del campo y en esta reunión de pastores pues se habla de muchas cosas

debates interesados en ocasiones la señora lópez de ocariz lo ha definido este que tratamos hoy como polémica que sin embargo no van a los retos a los que yo he hablado son debates que sí se centran en los medios en los medios como puede ser la marca como puede ser la denominación

que fue un debate que tuvimos en noviembre del año pasado o ahora sobre la representación de euskadi en esa denominación de origen el debate o la polémica hoy es si el representante del gobierno vasco trabaja o no trabaja si va o no va si tendría que ir la diputación o si tendría que ir el gobierno si va con voz si va con voto o si va con dos votos y son debates sobre los medios y no sobre los fines sobre los fines que nos deberían interesar sobre el bien común también tengo que reconocer y lo voy a decir expresamente que es mejor hablar de esto que no hablar porque no hablar es que parezca que no pasa nada y eso

su intención de traer este debate porque es mejor que hablemos al menos de esto que no que sigamos dejando que la oveja

eskumenak eskualdea garatzeko edo hortik jarraitzeko esto también lo dije en el anterior debate para qué debatimos cuál es el debate real para qué queremos la marca para qué queremos hoy en día estas competencias las queremos para mejorar para avanzar

de otros vinos para hacer vino de mejor calidad con mayor valor añadido para que sea un vino con mayor arraigo en la comarca para hacer una viticultura más sostenible para poder conseguir condiciones laborales más dignas para los trabajadores y las trabajadoras

la enmienda de nuestro grupo con ser insuficiente para la proponente lo que venía a decir es que las instituciones colaboren y se coordinen

que hablen entre ellas que hablen con la denominación de origen que hablen y que escuchen que escuchen a los agricultores y agricultoras y a las pequeñas bodegas que están desapareciendo apoyo y asistencia mutua mientras no se produzca este debate todo lo que tratemos en estos debates parciales seguirá siendo

aun así y yo tengo que reconocerle a la proponente la intención y la búsqueda que ha hecho de un acuerdo más amplio aunque solo sea por eso tengo que decir

votaremos a favor de la propuesta del partido popular porque no siendo suficiente al menos no se limita a callar y mirar para otro lado eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea les tengo que reconocer que a estas horas

tres mensajes y tres mensajes muy claros uno por el consejo regulador otro la actitud del gobierno y otro cómo no las necesidades o actitudes que tiene que tener el sector

desde luego estoy de acuerdo con mi compañero becerra en el que el tema es de fondo y sí hay que agradecer a la señora lópez de ocariz haber traído este tema aquí aunque la verdad tengo que reconocer también que creo que la

desde luego lo que decía tenía tres puntos y uno es la actitud del consejo regulador efectivamente podremos debatir cómo cómo hay que votar cómo hay que participar

escandalosa sigue siendo escandalosa porque está con un punto de obsesión y bajo unos intereses comerciales unos intereses políticos

y eso es así creo que esta semana más que cualquier otra lo hemos visto de primera mano y estamos viendo un punto de obsesión por esa centralización por ese querer controlar todo y por esa cerrazón que es o todo lo tengo yo o aquí nadie tiene nada

mucha más riqueza de país tenemos y en este caso pues el consejo regulador nos demuestra y nos da un golpe encima de la mesa diciéndonos que es ellos y nada más que ellos así que esta actitud yo diría que atacante bueno

no solamente sus decisiones sino las maneras también incluso de tomarlas cuando hablábamos aquí

buena fe del consejo regulador dudo desde luego no confío en ella

la actitud del gobierno vasco pues la actitud del gobierno vasco creo que hace pocas semanas lo debatíamos también aquí con el tema de marca rioja alavaesa ha estado desaparecido no porque no vaya a las últimas reuniones que en las últimas reuniones de estos últimos años no ha estado

pues ha quedado en evidencia que efectivamente el gobierno no estaba haciendo los deberes nosotros pedíamos algo muy concreto en nuestra enmienda de transacción

no sé si tanto ir a buscar un voto porque el ministerio creo que aquí nos lo responde pues no consideran su procedencia

no hace falta que el gobierno vote pero sí una actitud proactiva porque eso significaría que estamos defendiendo no solamente los intereses de la comarca de una comarca vasca y alavesa sino también de las bodegas familiares y pequeñas de rioja alavesa

diría que es una obligación defenderlo frente al consejo regulador incluso

la oportunidad que me va a dar hablar de la nueva denominación viñedos de álava arabako mahastiak y yo creo que eso es lo que le pedimos al gobierno vasco una actitud proactiva y que se mueva

y que yo sé que dentro del consejo regulador cambiar de actitud al propio consejo es imposible porque simplemente

es un poco complicado no desde luego

a las necesidades del sector a la defensa del sector digo que alavés pero más que alavés es familiar y de pequeñas bodegas en este caso alavesas y que desde luego que hay que participar en las reuniones bueno pues diría que les pagan para eso

la añada de vino ha sido excelente si nos quedamos así con eso décimos añada excelente el consejo regulador contento todo el mundo contento el gobierno contento la gente que compra el vino rioja también está contenta pero el sector la gente que está produciendo vino

no le ha supuesto nada quiero decir sí es excelente pero los precios de la uva han bajado el precio del vino ha bajado

para esa obsesión de la cantidad de vino que vamos a vender pero no siempre está unido a la calidad

sí que tiene dados encima de la mesa los tenemos todos y todas y es que en estos dos últimos años han desaparecido más de treinta y siete bodegas pequeñas estas que hablamos de cosecheros yo creo que es un dato que nos pone los pelos de punta como tal porque si por algo es famosa nuestra comarca es por ese

marca que este modelo este que impulsa el consejo regulador no es válido para todos y además voy a decir una cosa que se está intentando desviar el tema estamos hablando de un tema siempre

ciertos intereses políticos también diría periodísticos industriales como no

en cambiar un poco el en desviar el tema poner el foco en otro sitio y es porque hablan de

lo defiende euskal herria bildu porque estamos entre bodegas alavesas o españolas

es un tema de modelo es un tema de cantidad contra calidad es un tema de producir de crear comarca o de no y en eso el consejo regulador nos demuestra una vez más que desde luego ellos apuestan

o sea creo que esto es una política que hay que hacer país estamos todos en una trainera

entonces creo que esto es una política de país y ahí miro a la señora consejera que la tengo aquí delante porque

que arreglar mientras estemos cada uno tirándonos en manera

para acabar hoy no hablamos tanto de cómo vamos a funcionar en el consejo regulador que todos tenemos muy claro técnicamente cómo se funciona sino que vamos a hablar de respeto y de apoyo al sector a las bodegas familiares y a la comarca no tenemos otro remedio además

y que dice que cuatro bodegas de rioja alavesa están en el podio del gurú del vino tim atkin un crítico británico que es el que marca cuál es el vino bueno

que saca viene a lanzar una advertencia y una advertencia al establishment del rioja

y dice rioja necesita las pequeñas bodegas y familiares las necesita porque sin ellas rioja será una industria de primera pero será una región vinícola de segunda y nos lo advierte

británico creo que este parlamento se tiene que poner las pilas eskerrik asko eskerrik asko lopez de arroyabe andrea euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

en este parlamento tratando hoy este asunto es porque es un capítulo más de unos cuantos años

en los que hay un cierto malestar y un cierto desencaje a la hora de poner en valor lo que significa

rioja alavesa dentro de la del sector de la denominación

probablemente porque a pesar del peso de rioja alavesa cuantitativo y cualitativo en muchas ocasiones se considera que

regulador no potencian lo suficiente a esta zona

de rioja alavesa y efectivamente en los últimos años ha habido problemas

cómo se promocionan las calidades cómo se hace la política de precios otras decisiones que tienen que ver también con la calidad del vino y por lo tanto con la producción del vino ciertamente hay problemas y además

que es muy importante de rioja alavesa dentro del conjunto de rioja no tenía la consideración suficiente por parte del conjunto del sector

y que provocan de vez en cuando algunas iniciativas hoy esta anteriormente hemos tenido otras y que también otras polémicas pero yo creo que por lo menos a mí me parece importante lo que no debiéramos de hacer nunca es perder la perspectiva

es una historia de éxito y lo es primero porque tiene una producción importantísima de vino

muy potente porque tiene una calidad muy buena en algunos casos porque en rioja alavesa

hay vinos de calidad media

hay un volumen importante en la producción de rioja alavesa de vinos de calidad y por lo tanto se quiere que esa calidad se valorada

y esa historia de éxito nos hace producir

tener además una política de mercado con una exportación importantísima que es

a su vez el retorno a rioja alavesa a álava y a euskadi de ese potencial económico y social que

a este desarrollo del sector de rioja hay que decir que hay pequeñas medianas

que las pequeñas bodegas tienen un nicho de producción concreto y que el otro ochenta por ciento lo producen

hace su función unos tienen unos mercados otros tienen otros pero para que sea una historia de éxito efectivamente se necesita ese volumen y por lo tanto

sino que tiene que ser un encaje un encuadre entre todas ellas para que cada una que tiene su razón de ser y tiene su espacio

en la mejor rentabilidad y con la mejor perspectiva de futuro dicho esto

y lamento muchísimo que una vez más en este parlamento no seamos capaces de aparentemente estando de acuerdo con lo que significa este sector y lo que significa para la economía y lo que significa también como tarjeta de presentación del país y también como medio de abrir

y a otros muchos productos lamento que no seamos capaces de encontrar acuerdos de mínimos porque viendo la iniciativa y viendo las enmiendas de todos los grupos incluida la que hemos presentado el grupo nacionalista y el grupo socialista puede haber

y me parece más importante que haya lugares de encuentro de mínimos que el que al final aquí haya tres o cuatro posiciones diferentes

sobre algo que en el fondo se puede resumir en que todos compartimos en este parlamento o creo yo que todos competimos

que rioja alavesa no tiene el peso el valor el tratamiento el encaje que debiera de tener por su importancia en

y estamos por un lado y por otro tratando de abrir espacios caminos y uno de ellos es el que hemos presentado nosotros para buscar esa armonía la historia reciente del sector de rioja alavesa es una historia de desencuentros es una historia a la que como he dicho en más de una ocasión

empujar profesionalmente le falta empujar económica y socialmente

unidad de acción y de criterio en relación a esto y así nuevas iniciativas de las que hoy prefiero no hablar

no solamente entre nosotros sino también con el consejo regulador también entre instituciones también con el ministerio de agricultura y

yo creo que debiéramos de intentar seguir un poco esa especie de ruta

y es que normalmente se discute más después de beberlo aquí discutimos más antes de beberlo quizás debiéramos de discutir antes de beberlo y tratar de llegar a más acuerdos pero bueno hay quien sostiene que el vino es poesía embotellada vean ustedes

cada uno de los puntos del día pero cuando llega la hora de votar a algunos parlamentarios y parlamentarias no se les permite y tienen que resignarse a ver cómo otros y otras

que ponen pueden ejercer su derecho a voto no pues eso es lo que pasa cada pleno del consejo regulador

puede acudir siempre que sea invitado por el consejo

los estatutos del consejo regulador establecen que serán invitados al pleno cuando se estime

los representantes de las comunidades autónomas de la rioja país vasco y navarra además del ministerio de agricultura desde nuestro grupo consideramos que esa invitación a la participación pues no es suficiente porque no lleva a ningún lado no se puede condicionar ni tomar parte ni incidir en decisiones que son clave para nuestros viticultores y bodegueros alaveses es esencial que la representación de las administraciones públicas sea con voz y voto si no nos sirve absolutamente de nada así es como se logra esa presencia activa y determinante en la toma de decisiones del consejo la utilidad está en el voto no votar es decir amén

representa y defiende los derechos y los intereses de todos los viticultores y bodegueros de rioja alavesa en los plenos del consejo y allá donde sea necesario y en contra de lo que se ha comentado aquí

a los intereses de los alaveses y alavesas pero eso sí en ningún momento puede votar en lo que se refiere a la representación de los agricultores en el consejo

ni las pequeñas bodegas ni las medianas se ven defendidas ahí con sus intereses y eso lo dicen los datos pero también la mayoría de los viticultores de rioja alavesa cuando son preguntados por ello cuarenta bodegas se hacen con el ochenta y tres por ciento de la comercialización de rioja lo que implica que quedan más de quinientos cincuenta bodegas que tienen que competir por ese veinte por ciento restante esa es la realidad económica de la denominación de origen defendida por el consejo regulador

con esas cifras tan desequilibradas los viticultores alaveses en minoría en el consejo se la juegan con las decisiones que otros toman por ellos y que afectan a sus viñedos a su forma de trabajar a su forma de elaborar a su forma de comercializar no es justo que no se les tenga en cuenta como se merecen

las pequeñas bodegas hacen que los pueblos sigan vivos si abandonan se mueren hay que buscar ese equilibrio entre las grandes bodegas y las pequeñas y se trata

rioja alavesa es singular es diferente por sus características de suelo por sus viñedos por su clima por sus cosecheros por su modelo de bodega familiar por su forma de elaborar por muchísimos matices está claramente diferenciada del resto de las zonas o subzonas de la denominación

y eso además de condicionar su manera de trabajar supone unos costes de producción mucho más elaborados que en el resto de rioja

no se le puede dar la espalda a esa realidad tratándola como a otra más en rioja alavesa conviven muchas realidades diferentes

nadie querría buscar otras alternativas el consejo tiene que abandonar su estrategia recentralizadora unificadora porque las formas de producir y elaborar los vinos son diferentes no puede dar la misma respuesta a una bodega familiar que hace una crianza de cinco mil botellas con su propia uva o a otra que hace cincuenta mil por ejemplo con uva

esa homogenización está causando importantes problemas a los viticultores alaveses

las que controlan el consejo y son las que manejan grandes volúmenes de producción y su modelo de negocio es incompatible con el modelo alavés que prima la calidad frente a la cantidad

gainerakoen eskakizunek sekulako oztopoa suposatzen dute hace poco debatíamos en este parlamento el despropósito que el consejo regulador llevó a cabo con el registro de la marca rioja alavesa parece que nos tiene más que acostumbrados y acostumbradas a sus extralimitaciones de proteger promover comercializar y controlar la productividad y la calidad del vino lleva tiempo tratando de invadir competencias como la turística que es exclusiva del gobierno vasco y el consejo ha puesto en marcha una estrategia

enoturística que vuelve a homogeneizar la oferta turística tratando a rioja como un todo

igual de visitable cuando son muchas las instituciones vascas que llevan años trabajando para potenciar el turismo en rioja alavesa

jada arabar errioxan en fin en definitiva

a todas estas cuestiones y habrá que hacerlo como hasta ahora manteniendo una forma de hacer una identidad por todo ello es necesario un cambio de modelo en la relación entre el consejo por qué la mayoría de los agricultores alaveses

en un proyecto que también les corresponde pues habría que hacer una reflexión no y hay que abordar esa cuestión teniendo en cuenta

las necesidades de sus protagonistas que son los viticultores y los bodegueros de rioja alavesa ellos deben decidir su futuro futuro que lleva años demandando y que pasa por la diferenciación

para seguir poniendo en valor la calidad de los vinos y que puedan tomar parte de las decisiones sobre las variedades la producción el etiquetado o la comercialización y cualquier medida que afecte a su modelo de negocio

a que estudien la modificación de los estatutos para que puedan acudir nuestros representantes al consejo con voz y voto y además

una propuesta mucho más ambiciosa que la original porque consideramos importante la presencia de las dos instituciones más cuando se trata de un órgano en el que se toman decisiones

y sus viticultores y bodegueros y es imprescindible estar con voz y voto decía la señora lópez de ocariz que antes no solicitábamos el voto y ahora sí evidentemente

cada vez es más importante y necesario tener presencia en el consejo regulador porque cada vez es más abusivo con los agricultores alaveses y hay que estar defendiendo los intereses y la diferenciación que no tienen en cuenta de rioja alavesa además es necesaria esa presencia porque las dos instituciones el estatuto y la ley de territorios históricos confieren competencias a las más de

de viñedo que hay en rioja alavesa la diputación que por cierto ayudó y mucho a la creación de la denominación tiene competencia en producción y gobierno vasco en promoción y comercialización

por aquí también que el ministerio ya ha respondido que no lo va a hacer que no va a cambiar los estatutos bueno y porque el ministerio nos diga que no nos vamos a rendir

solicitando las competencias que sí nos corresponden y no por eso dejamos de hacerlo por lo tanto nosotros insistimos

y en este caso de los intereses de los viticultores y bodegueros de rioja alavesa y está claro que hay que buscar nuevas fórmulas para revertir esta situación para frenar al consejo y volver a apostar por la calidad pero cuando todo un sector reclama el cambio

si es necesario estar por qué no van me pregunto es necesario pues no van

porque no hay un ánimo constructivo en este gobierno no hay un ánimo de gestión responsable estamos al momento al titular a la situación a la campaña electoral del momento a eso estamos no estamos a una gestión responsable

permanente especialmente en los siete últimos años hacia la denominación de origen calificada rioja lleva años este gobierno provocando la división la ruptura de la denominación de origen calificada rioja

esta denominación rioja que afecta a una zona

en este caso elevan su enredo al ministerio madrid tiene la culpa si no el consejo tiene la culpa mire esto es muy viejo muy casposo esto es del siglo pasado huele huele y huele no son creíbles con este argumento qué hace el gobierno qué hace el gobierno pues el gobierno coge un texto que alguien le ha presentado

no compartido que no sabe quién lo apoya y lo eleva al boletín claro hay que elevar todo bien alto al boletín y esto dicen que es porque hay que

una propuesta que fíjese usted con todo lo importante que debe ser no tiene cara y ojos sí sí tiene cara y ojos lo expuso ayer la señora consejera es la única cara y ojos que ha salido a defender

la única con el apoyo del señor lehendakari no hay dónde qué productores apoyan esto dónde están que no ha pasado este documento por una asamblea de la propia asociación y esto es oscuro es un documento incompleto porque no se han complementado todas las alegaciones que pedía la diputación de álava mire

es la zona rural de todo el país vasco con mayor proyección de futuro

un alto volumen de relevo generacional en el sector primario tiene un potencial turístico importantísimo y resulta que por un documento que no sabemos ni quién lo ha elaborado que parece que es el propio gobierno vasco

ponen en riesgo el trabajo y el futuro y la economía de una zona con once mil quinientos habitantes

del año dos mil dieciocho por ejemplo que han sido ponen en riesgo la producción

viticultores la producción y la elaboración de trescientos cuarenta bodegas pero qué frivolidad es esta señorías qué frivolidad todo por ver qué espacio de poder ocupa

ni la rioja ni nada ni sus habitantes ni los trabajadores ni el potencial turístico o industrial que hay en la zona no les importa absolutamente

van a sus intereses partidistas y particulares los problemas que tiene para la exportación los retos que tiene en este momento el sector vitivinícola especialmente

porque estamos todo el día atacándole y principalmente desde la institución mayor de esta comunidad autónoma que es el gobierno vasco

merma la capacidad económica de este sector el consumidor

porque ustedes siembran la duda encima de esta denominación de origen y eso lo que provoca es que sea cada vez menos atractivo hay otros

pero que son tratados con mayor mimo con mayor cariño en valor todo lo que contienen y todas las administraciones trabajan al unísono aquí no aquí vamos al contrario y quién pierde pierden los productores pierde la denominación pierde valor el producto que es el vino de rioja ese que dice que tanto quiere bueno

están todo el día criticando y poniendo en cuestión cada acción del consejo del ministerio de todo el que pasa por allá menos ustedes
que son los principales dinamitadores de la denominación de origen rioja eskerrik asko lópez de ocariz andrea

bueno pues bienvenidos a la última reunión de pastores la señora lópez de ocariz le echa la culpa a abra y al partido nacionalista el partido nacionalista le echa la culpa a madrid

y el partido socialista le echa la culpa a la ideología política

del auténtico problema y todos ustedes han dicho cosas que son verdad

a que el gobierno vasco tenga un voto un voto en un consejo que tiene cien

cuán determinante es un voto señora molina usted ha dicho es determinante que tengamos un voto un voto de cien

sería interesante que lo tuviera pero ninguna institución tiene voto en ningún consejo de denominación ninguna por ejemplo en el de txakoli de araba no tiene voto el gobierno vasco ni la diputación usted ha dicho señor

que la historia de rioja es una historia de éxito también hay que decir que los éxitos son efímeros el éxito de hoy puede ser el fracaso de mañana

el problema es que estamos compitiendo por un mercado cada vez más menguante al que se había intentado escapar a través de la exportación y la exportación nos la están menguando gente como trump o el brexit

el grande se come al pequeño y ese es el problema ya lo ha dicho en la señora lopez de arroyabe treinta y siete pequeñas bodegas han desaparecido treinta y siete cosecheros

si esperamos a que tengan su nicho para cuando estemos ya no estará la oveja

uno de los problemas es vender por precio vender a precios bajos efectivamente ese es un problema muy grande pero

riojana porque señora lopez de arroyabe en rioja alavesa

y entonces crear una marca en rioja alavesa nos llevaría a que si en la denominación de rioja de origen rioja

en rioja alavesa veinte tendrían el setenta y cinco por ciento es decir que creando una marca nueva replicaríamos el mismo modelo tendríamos unas bodegas

y un montón de bodegas pequeñas en este caso doscientos a las que les comen el mercado entonces la marca en sí la marca en sí

en sí mismo no es una solución si no va a hacer algo diferente porque usted ha dicho hagámosle frente al consejo regulador el consejo regulador es una marca consolida conocida en todo el mundo mi pregunta es se le puede hacer frente al consejo regulador

igual hay que buscar otra vía qué tal si buscamos la vía de la colaboración si se puede seamos prácticos porque efectivamente

esto debería ser una política de país pero la política de país se hace diseñando

hacia dónde vamos y ese es el debate que hoy una vez más no hemos vuelto a tener hemos tenido una reunión de pastores y en una reunión de pastores
ya se sabe que nunca sale nada eskerik asko becerra jauna

bai kaixo berriro les tengo que reconocer que me han alegrado el día porque de tanto hablar de vino

del vino alavés en este caso y de verdad el inicio

en una montaña rusa subiendo bajando y hemos acabado hablando de una cosa que no era lo que nos trae hoy aquí pero yo estoy encantada estoy encantada porque me da paso

su explicación las cosas como son y si no diría lo contrario pero hoy estamos hablando aquí de esa famosa marca ya que se ha hecho famosa esta semana de esa marca que no va contra nadie que simplemente habla de respeto que habla de alternativas y que habla de respeto no sé si a su asamblea a la asociación a las personas o bodegas familiares y pequeñas de esa asociación que han pedido diferenciarse que ya lo pidieron hace dos años y el consejo regulador

por eso dos años después el gobierno no ha hecho nada más que algo técnico que es poner en marcha lo que se le había pedido listo listo aquí no se trata ni de juzgar

con su dinero está intentando llegar a fin de mes de la gente con sus uvas qué puede hacer con ellas o con su vino si lo etiquetamos y lo vendemos en shanghai o lo vendemos en bilbao eso es lo que estamos hoy hablando aquí

esta iniciativa nueva de viñedos de álava no suma o sea solo suma no resta crea alternativas no va contra nadie

esto no es cuestión de nacionalismos es cuestión de sobrevivir ya está ya está rioja alavesa pertenece a quienes viven y trabajan allá a nadie más

ni a un partido político siquiera a nadie ni una o sea a nadie pertenece a quienes están allá y quienes mantienen el territorio quienes mantienen los pueblos quienes trabajan y viven allá porque esas personas sí que están viviendo y trabajando allá y creando economía

y que desde luego venden a precio eso sí que no desde luego le reconozco que

para no haber puesto yo ninguna intención en esta iniciativa me alegro que se haya dado el debate y

pero sobre todo me gusta que el gobierno nos diga claramente qué va a hacer o qué no va a hacer eskerrik asko eskerrik asko lopez

señora lópez de ocariz ha dicho usted en su primera intervención que se ha animado a presentar esta iniciativa por la presencia o no del viceconsejero en los plenos del consejo regulador o sea no se ha animado porque el consejo invada competencias y ningunee a los alaveses interesante

ya le dicho que gobierno vasco defiende los intereses de los alaveses donde tiene que hacerlo y dice usted

de del consejo bueno ya sabemos que ustedes defienden a ese consejo porque comparten esa obsesión

pero es que son los bodegueros los que están demandando más presencia en el consejo y un cambio y no un pequeño cambio un gran cambio para su modelo económico

que es la política que está desarrollando ahora el consejo

porque el gobierno vasco ha hecho un trámite administrativo que tiene que hacer si no quiere

y el señor becerra

dice que total un voto un voto más un voto menos no menos determinante será no votar digo yo pero bueno

a que usted ahora mismo no vote en este punto que vamos a hacer porque